euskal sisteman como todos ustedes saben cada una de estas políticas públicas tiene

una nueva regulación de fondo de las tres materias pero ninguna para su alcance presupuestario

sigue siendo un bloque normativo de carácter unitario conciso en sus contenidos y de materia presupuestaria estricta y todo ello a pesar de ser tres las iniciativas diferentes en la forma diferenciación que como anticipé la semana pasada en el momento de aprobación

se ha hecho para eludir el serio riesgo de que los grupos políticos de oposición en esta cámara impidan que las medidas contempladas en un único proyecto legislativo

seguramente por motivos muy ajenos a las regulaciones propuestas y a sus contenidos no abundaré sobre las cuestiones de forma que nos han traído hasta esta situación de tener que lidiar con tres iniciativas de

tal y como corroboró el informe de legalidad elaborado por esta misma cámara pero llegados a este punto también es bueno que cada grupo pueda manifestar su opinión

ideológica que cada iniciativa le motive este gobierno sabe que no tiene presupuestos para el año diecinueve sabe también

y sabe mejor que nadie que tiene que seguir gobernando este ejercicio con una prórroga presupuestaria una prórroga que con sus claras limitaciones ha de ser afrontada desde la responsabilidad responsabilidad que hace que determinadas políticas necesitadas de ley para su puesta en marcha deban ser

y como en mi opinión procede ahora no son políticas menores pero sobre todo son políticas insoslayables para un actuar coherente

de nuestra sociedad o esto es lo que pensaba el gobierno cuando propuso de manera absolutamente normal unos contenidos intrínsecamente positivos equilibrados en su conjunto para con las posiciones políticas

sin ningún abuso normativo y con un modelo de tramitación parlamentaria ágil lo que no podía es reproducirse la discusión presupuestaria ya que esta no cabía ya había tenido lugar esto no es el presupuesto

pero limitadas y directas con las que se puede estar de acuerdo o lo contrario pero que no requieren una negociación al no caber además

salvo el tema de la renta de garantía de ingresos máximos legales a los que se puede acceder son medidas para un periodo limitado de tiempo en tránsito hacía las regulaciones generales de cada política pública

esperemos más pronto que tarde en lo que toca a los proyectos concretos y sus contenidos

que no se sepa ya yo mismo los he presentado en la comisión del proyecto de presupuestos generales del ejercicio diecinueve el seis de noviembre del año dieciocho

es por ello que me referiré brevemente lo ya transcrito en las memorias de los proyectos que se acompañan como documentación parlamentaria y que todos ustedes presumo que conocen bien en su conjunto

el establecimiento de una serie de disposiciones que vienen a complementar

determinados gastos para los cuales no existe habilitación en el presupuesto prorrogado

y que de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de euskadi requieren la concesión de créditos adicionales y por lo tanto

así en el primero de ellos se procede a la actualización de determinadas autorizaciones de gasto destinadas al incremento de las retribuciones de personal y de los haberes pasivos

también procede a fijar la dotación presupuestaria del parlamento vasco para el ejercicio dos mil diecinueve de conformidad con el presupuesto aprobado

actualiza la cuantía de las tasas para el presente ejercicio con un incremento del uno coma cinco por ciento con respecto a la cuantía que resulta exigible el año dieciocho todo ello se completa con varias disposiciones que habilitan al gobierno y al departamento de hacienda y economía

que sean necesarias hasta el límite de las aportaciones previstas para el presente ejercicio y con la garantía de cumplir los parámetros de estabilidad presupuestaria

este proyecto permitirá afrontar las subidas salariales de los funcionarios y laborales de la administración de la comunidad autónoma de euskadi y atender además con suficiencia

básicamente además abre todas las posibilidades permitidas por la legislación básica en la materia y las amplia hasta el máximo posible

el año anterior como es el caso de la administración vasca

modifica el régimen general de prórroga y no condena al funcionario vasco a una subida salarial mimética

el resto de las regulaciones incluidas en la ley son también importantes si bien desde el punto de vista estrictamente crediticio son más adjetivas así la dotación del parlamento vasco con una subida inferior a uno millón de euros respecto al año dieciocho

menos de medio millón de euros de incremento en el estado de ingresos son dos medidas testimoniales que también requieren de ley y en el primer caso de créditos adicionales en el segundo de los proyectos de ley se procede a la fijación de la dotación presupuestaria para la universidad del país vasco

de conformidad con lo que disponen los artículos noventa a noventa y tres de la ley tres barra dos mil cuatro de veinticinco de febrero del sistema universitario vasco también se actualizan los componentes de los gastos de personal

para el presente ejercicio finalizando con la habilitación al gobierno para realizar las operaciones presupuestarias que sean necesarias a tales efectos se trata de unas medidas que tradicionalmente forman parte del contenido de las leyes de presupuestos generales y en su defecto de las leyes de medidas presupuestarias a las aprobadas en ejercicios anteriores por un lado tal y como dispone la ley del sistema universitario vasco la dotación anual a la upv

por el gobierno para cada ejercicio presupuestario e incluida en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma a falta de dicho proyecto de ley

en una ley de medidas de esta naturaleza a los efectos de proceder a la fijación de la dotación necesaria para el presente ejercicio sin proceder a la prórroga de la dotación prevista en el dos mil dieciocho por otro lado en el caso de los módulos

la actualización de sus cuantías para el ejercicio dos mil diecinueve posibilita la

de la subida salarial del personal público docente no universitario

desde la ley y si bien esta es una medida de carácter estrictamente presupuestario es conocido que el gobierno lleva tiempo trabajando en medidas que pudieran ayudar a afrontar la realidad demográfica o fortalecer

de la educación especial para contribuir a la mejora educativa y ayudar a la normalización de la actividad en la escuela concertada por último el tercero de los proyectos de ley contempla dos medidas de política social

así a través de este proyecto por un lado se procede a la actualización de las cuantías de la renta de garantía

y de subsidio mensual complementario para unidades de convivencia monoparentales

no obstante dicho incremento será del cuatro coma cinco

de convivencia constituidas por personas perceptoras de pensiones

el proyecto de ley contempla un incremento superior al previsto en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio diecinueve

en la administración vasca se trata en opinión del gobierno de un incremento

en el presente ejercicio en espera de la regulación definitiva que pueda aprobar este parlamento a partir de la proposición de ley actualmente en tramitación

porcentual puede señalarse que el considerable incremento experimentado por el salario mínimo interprofesional para el ejercicio dos mil diecinueve permite acometer una mayor

sin que dicha medida sea directamente desincentivadora de la búsqueda de empleo para los perceptores de dicha prestación en edad de trabajar

que esta variación porcentual ahora propuesta también obedece a la voluntad del gobierno de suscitar el mayor consenso posible

de estas prestaciones dirigidas a los colectivos más desfavorecidos haciendo un especial esfuerzo en las personas pensionistas perceptoras de la renta de garantía

desde la seguridad de que ninguno de los grupos de la oposición es capaz de suscitar un consenso superior al del gobierno en este parlamento en torno a esta cuestión creemos sinceramente que una propuesta para el consenso es creemos que es una propuesta muy razonable para la generalidad de las fuerzas políticas aquí presentes probablemente sin contentar del todo a nadie pero sin que se condenase a los perceptores de la renta de garantía de ingresos a una subida de uno coma cinco por ciento idéntica a la del ejercicio anterior sean perceptores

o no quiero entender que a tenor de las manifestaciones hechas días atrás por algún grupo político así se ha apreciado cosa que agradezco

por otro lado este proyecto de ley también prevé la derogación de la disposición adicional sexta de la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil dieciocho norma legal aplicable en virtud del régimen de prórroga durante

esta disposición introducida por primera vez en el ejercicio dos mil doce con la finalidad de contener el déficit hace referencia a la reducción de la cuantía de determinadas ayudas

a la reducción en un cinco por ciento de las prestaciones establecidas

de veintinueve de junio sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral

para la financiación de las medidas de gasto previstas en los tres proyectos de ley que ascienden a una cantidad de entorno de doscientos cuarenta y siete millónes de euros

con cargo a los ingresos obtenidos por las mayores aportaciones previstas para este ejercicio diecinueve por el consejo vasco de finanzas públicas de octubre

la disposición de mayores ingresos durante el presente ejercicio permite en consecuencia proceder a la financiación de las medidas previstas

el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la comunidad autónoma de euskadi

hasta aquí el contenido de los proyectos pero no quisiera terminar esta intervención

sobre el procedimiento abreviado elegido por el gobierno para la tramitación de esta norma ciertamente ha resultado un tanto sorprendente la crítica y el recelo con la que

para la en principio única ley que incorporaba las medidas de corte presupuestario ahora presentadas y digo sorprendente porque ni es la primera vez en esta legislatura que se ha usado este procedimiento reglamentario ni en las legislaturas anteriores ha resultado una cuestión extraña y nunca ha sido cuestionado

otorga al ejecutivo máxime cuando este carece de la facultad de dictar decretos leyes

rotundamente refrendada por los servicios jurídicos de esta cámara hizo precisamente que el contenido del proyecto ahora proyectos fuera de mínimos es decir sin incluir medidas presupuestarias y desorbitantes sin por menores de gastos departamentales

sustancialmente los créditos prorrogados además este gobierno informó varias veces a los grupos de la oposición de su contenido

con el fin de recabar su opinión en relación al contenido de las medidas y la viabilidad de su aprobación

no se trataba como he señalado anteriormente de reabrir el debate y la negociación sobre el contenido y alcance de los presupuestos para el presente ejercicio sino de pulsar la opinión de los grupos de la oposición en torno a la aplicación de estas medidas y en lo posible

o apoyo de cara a la aprobación de dichas medidas por este parlamento

también debo decir que ninguno de estos grupos planteó durante las conversaciones mantenidas con los mismos reservas u objeciones en torno al contenido elegido ni tampoco propuso la eventual inclusión de otras medidas de naturaleza similar por lo tanto difícilmente puede acusarse al gobierno de pretender actuar

a debatir o a enmendar las iniciativas legislativas del gobierno

haberse cuestionado este procedimiento de lectura y votación única en la convalidación de reales decretos leyes con similar contenido en otras cámaras parlamentarias e incluso

onuragarriak direla ulertuko duzuela creo que no es tiempo de mirar al procedimiento y si procede ser conscientes de que estas medidas

familias vascas creemos que son medidas positivas

la humildad debida vengo a pedirles su apoyo a estos proyectos de ley en la seguridad

lehendakari jauna señores consejeras y consejeros señorías buenos días

y aun a sabiendas por parte de todos que lo que se estaba haciendo era ajustado

costamos a la ciudadanía ha llegado el día en el que tenemos que decir qué queremos hacer con los recursos qué disponemos en una situación de prórroga presupuestaria y el grupo socialista viene a este pleno con vocación de dar certidumbre y respuestas

que en dos mil dieciocho fueron perceptoras de la renta de garantía de ingresos y que esperan de su gobierno responsabilidad para atender sus demandas

venimos al parlamento hoy con la intención de que los mayores recursos económicos de la ciudadanía que ha dejado en manos del gobierno una serie de recursos a través de sus impuestos se les devuelvan en forma de mayores ingresos retributivos

mayor actividad económica en euskadi pretendemos que se les devuelva

y de mayor también inversión social en definitiva lo que pretendemos es promover un retorno cercano a los doscientos cincuenta millónes de euros a la ciudadanía y creemos necesario que ese retorno económico y social a la ciudadanía

en la exclusiva competencia del gobierno que es la de proponer las medidas económicas que hagan posible esos compromisos en una responsabilidad compartida

elegidas y elegidos por la ciudadanía para representarla de modo y manera que las decisiones que tomemos hoy tengan reflejo en la mejora de la vida

ese retorno porque el gobierno vasco va a contar con más recursos económicos porque en contra de lo que algunos se empeñaron en decir fuera y dentro de esta cámara

desde supuestas purezas izquierdistas ha demostrado que era eficaz y que era justa porque ha avanzado en progresividad ha avanzado

y ha tenido especial relevancia en el impuesto de sociedades

estos debido a una prórroga queden en la caja de la tesorería y no se devuelvan a la ciudadanía

para sus vidas no es comprensible para los socialistas vascos que cuando más se puede influir en las cuentas del gobierno se renuncie

los socialistas no aceptamos la condena la resignación del gobierno en el que participamos que algunos además

y hoy también seguramente tendremos ocasión de oír así lo dijimos cuando se fue al traste la posibilidad de un acuerdo presupuestario hace dos meses en el mes de diciembre

y que nadie se confunda aquella negociación por capítulos no fructificó lamentablemente pero allí acabó la negociación aunque algunas decisiones

para elkarrekin podemos la negociación acabó hace más de dos años cuando empezó la legislatura y decidió quedarse en un rincón en donde nada pudiera comprometerle

popular la negociación presupuestaria para dos mil diecinueve había acabado el día uno de junio porque se quería tomar la revancha con el partido nacionalista vasco y no había digerido para entonces la investidura del presidente pedro sánchez y para euskal herria bildu

acabó cuando quiso reconducir esa negociación a una suerte de sistema de pensiones vasco alternativo al que tenemos valiéndose para ello

jubiladas los socialistas vascos no hemos querido nunca quedarnos en la comodidad del escaño y quienes miramos desde euskadi lo que pasa

y quienes no queremos engañar a los pensionistas nos dedicamos a trabajar para que decenas de miles de vascos no se vieran perjudicados por las legítimas aunque cuestionables decisiones políticas de otros

y los dos proyectos de ley que veremos a continuación un procedimiento que siempre se ha utilizado el que han utilizado los gobiernos de los lehendakaris ibarretxe

el que han utilizado gobiernos en los que estábamos los socialistas o el partido nacionalista vasco

o ezker anitza y entrando ya en el contenido de este proyecto de ley referido al incremento de la renta de garantía de ingresos y a la derogación de la disposición adicional

los socialistas consideramos que es un capítulo social orientado a quienes menos tienen a quienes necesitan ese apoyo más urgente de la administración pública vasca a esas cincuenta y cinco mil trescientos ochenta personas y en este asunto no hay engaño

el que no pudo seguir adelante ya contemplaba estas dos cuestiones aunque en el caso de la renta de garantía de ingresos es cierto que con un incremento más moderado que ya ha explicado el consejero de hacienda a qué obedece el incremento que ahora se propone

a la elaboración del proyecto presupuestario y durante su tramitación

y que algunos parece que se les ha olvidado permitía un mayor compromiso de solidaridad y así se trasladó al único grupo parlamentario que se prestó a la negociación presupuestaria para dos mil diecinueve y también se le trasladó a euskal herria bildu en ese momento de negociación que no es el actual

que fue la propuesta que en realidad realizó euskal herria bildu con esa idea de individualización que no tiene que ver con el modelo de renta de garantía de ingresos que actualmente tenemos en vigor y digo que tenemos en vigor porque si de los socialistas vascos hubiera dependido este sistema de protección se habría reformado ya a partir de la propuesta que tenemos registrada

si por los socialistas vascos hubiese sido habríamos perfeccionado ese modelo con una clara distinción entre quienes tienen que recurrir a la renta de garantía de ingresos pero aspiran sobre todo a dejar de depender de ella y quienes por su condición de pensionistas no tienen expectativas de mejorar sus ingresos si no es a través de este complemento si por los socialistas hubiese sido tendríamos ya un modelo que garantizase

junto con el complemento de vivienda de doscientos cincuenta euros porque eso es lo que está previsto

que euskal herria bildu y otros grupos parlamentarios pidieron

y al partido nacionalista vasco que dejáramos aparcada de momento y es lo que estamos hablando con todos los grupos parlamentarios sin excepción para ver si somos capaces de encauzar este asunto en un modelo que de verdad sirva para el colectivo

vasca sabiendo que tenemos nuestras diferencias pero sabiendo también que sobre todo lo que nos une a esta gran mayoría que hay en la cámara es la convicción

y esa era nuestra idea y a ella nos aproximamos sin esperar a la reforma en ese proyecto de ley que hoy vamos a tener ocasión de votar no es todo lo que quisieran algunos grupos pero sí creo que no debemos desdeñar esos incrementos económicos

que son como digo los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad

no hay duda de ello y es muy legítimo pero el momento y las razones negociadoras ya se dieron

un acuerdo y se puede aspirar a otro modelo social como no y esa aspiración está en una mesa de conversaciones a parte de este

se puede aspirar a conformarse cómo no también con un incremento

si no se aprueba la propuesta que estamos hoy debatiendo se puede también conformar con

para los pensionistas si llegamos a aprobar esta propuesta si aquí se dan razones

cada cual desde el grupo socialista esperamos que se dé esta oportunidad de mejora para los colectivos más vulnerables el partido popular ha dicho públicamente que no se explica el porqué del incremento de la renta de garantía de ingresos que es mayor que el de los salarios de los funcionarios que el de la subida de los ingresos medios de los trabajadores y que es una discriminación

están cotizando y nos parece un argumento bastante incomprensible para oponerse a este proyecto de ley nos parece incomprensible en un partido que se considera a sí mismo como de orden y de estabilidad a pesar del despropósito fiscal que acaba de organizar en álava de la mano de orain araba y de bildu desconociendo que la gran mayoría de las persona perceptoras de la renta de garantía de ingresos

son mujeres son el cincuenta y siete coma ocho por ciento de las perceptoras de la renta de garantía de ingresos en dos mil dieciocho

mala por su precariedad económica y laboral por sus dificultades de acceso al mercado laboral porque no pueden o no les dejan cotizar en condiciones parece incompresible que no se tenga en cuenta que esas cincuenta y cinco mil trescientos ochenta personas actualmente perceptoras junto

pensionistas hay también además más de diez mil personas que son que cotizan que realmente cotizan pero con sueldos tan ínfimos que tienen que ver complementado sus ingresos gracias entre otras cosas a la reforma laboral de la cual sí sabe algo más el partido popular y resulta incomprensible que el argumento que utilizan

mayores de cincuenta y cinco años en su mayoría parados de larga duración esos a los que el gobierno

dejó sin subsidio y que ha tenido que ser recuperado por el gobierno de españa de pedro sánchez y que no habrían tenido otro recurso económico si no fuera esta renta de garantía de ingresos

para familias monoparentales y yo quisiera saber por qué no tiene consideración el partido popular

en los y las perceptoras de la renta de garantía de ingresos cuando las circunstancias económicas del gobierno permiten un esfuerzo mayor un esfuerzo solidario

por ciento la renta de garantía de ingresos el argumento que han venido empleando resulta además bastante incomprensible hasta insultante diría yo

y menos últimamente el empeño de los socialistas no es convertir a los perceptores de la renta de garantía de ingresos en un colectivo subsidiario y permanente nuestro objetivo es seguir dándoles oportunidad para que se incorporen al mercado laboral y que lo hagan en condiciones por eso es importante la subida del salario mínimo interprofesional por eso es importante el plan de lucha contra el fraude laboral que ha regularizado miles de contratos en euskadi

contra la brecha salarial y ya hemos conseguido en dos años de legislatura aquí en euskadi que empiecen a encontrarse

dejen de tener esa dependencia en la renta de garantía de ingresos y en la reforma propuesta de la renta de garantía de ingresos queremos profundizar

pero mientras tanto mientras logramos ese objetivo los socialistas seguimos empeñados en que nadie puede quedar abandonado a su suerte en que a nadie le pueden faltar

mínimos decentes y dignos y en que estamos convencidos también de que esos ingresos deben actualizarse e incrementarse en la medida de las posibilidades económicas

desde el gobierno vasco y desde el gobierno de españa para cumplir con uno de los compromisos que aprobamos en marzo del año pasado en este parlamento sin el apoyo por cierto del partido popular instando a que la recuperación económica llegue a la ciudadanía en general priorizando a los colectivos más desfavorecidos o que peor lo han pasado en los años de la crisis económica porque no se trata de derrochar o de malgastar el dinero público

algún grupo político algún grupo parlamentario como el partido popular de lo que se trata de lo que estamos debatiendo es de tener un compromiso activo con la solidaridad y la cohesión social en euskadi luchando contra la vulnerabilidad económica y contra la vulnerabilidad social

que hoy los socialistas vascos vamos a apoyar en esta cámara la de invertir en la cohesión social la del alivio la de procurar alivio a miles de familias

y con el consenso suficiente y para eso pedimos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta propuesta muchas gracias

utziezina irrenunciabilidad de las competencias ez dakit

el tren de alta velocidad vuelve a figuraren los presupuestos del estado para que llegue en el dos mil veintitrés en vez de en el dos mil veinticinco

y otros impuestos que estaban previstos tampoco por lo tanto no empezamos mal el día de hoy nos encontramos en un trámite al menos peculiar porque en estos momentos tenemos cinco proyectos de ley proposiciones de ley

hoy vamos a ver tres y quedarán dos y digo yo que es cuando menos raro cinco proyectos de ley de los cuales versan sobre las mismas cuestiones pero bueno hoy estamos en esta

nosotros no hemos discutido la fórmula que ha elegido el gobierno vasco es una decisión del gobierno

no estar muy de acuerdo con la urgencia de algunas medidas en la fórmula elegida por el gobierno por ejemplo ahora que estamos hablando de la rgi cuál es la urgencia para subir el tres

por qué es urgente alguien me lo puede explicar pues no no le he oído a ninguno de los grupos que apoyan al gobierno por qué es urgente de repente subir la rgi

la opinión a los grupos y nosotros de la dimos señora gorospe

de lo que él nos dijo le dijimos dos cosas una no nos gusta

y dos la concertada está infradotada

cuál fue la decisión del gobierno mantenerlas y traerlo por lectura única y qué le dijimos

no hemos mostrados ninguna actitud obstruccionista no nos hemos negado dijimos que le votábamos a favor

que el propio gobierno vasco traía del dos coma veinticinco en los presupuestos para este año hace un mes

y ahora de repente es urgente que suba al tres coma cinco este es su modelo

yo no sé si es consciente que está en minoría nos dice no hemos traído las propuestas que más consenso que puede tener oiga pues nosotros le dijimos antes de que lo trajera que le íbamos a votar que no fíjese qué consenso

con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo nos va a decir usted en qué tenemos que estar de acuerdo o este gobierno nos va a decir en qué tenemos que estar de acuerdo pues evidentemente

en minoría que ha utilizado la técnica del trágala y además ha tomado de rehenes a los funcionarios

cómo les van a perjudicar a los funcionarios aquí metemos la rgi

que por cierto estamos en el mes de marzo y en el mes de enero les podían haber subido el uno coma siete que estaba previsto

en enero les podían haber subido el uno coma siete no lo han hecho no lo ha hecho este gobierno ha incumplido la ley

hay alguna medida que nos haya propuesto este gobierno en estos tres proyectos de ley

alguna alguna ninguna

nos hablaba de las bondades de nuestro sistema de la renta de garantía de ingresos y yo no le voy a discutir las bondades pero le puedo hablar de las no tan bondades cómo es posible que tengamos el doble

que no sé si tiene cuatro o tres veces más población que nosotros y casi el triple que la andaluza que no se cuanta población tiene

y no creo yo que andalucía sea un dechado de comunidad autónoma rica

fantástico y ganen mucho dinero porque el nivel de paro

algo parece que no cuadra bien en estas cosas o que nos hable usted de los parados de larga duración que están en lanbide y no será que lanbide no funciona y que es incapaz

y eso de quién es responsabilidad de las leyes laborales o de la incapacidad de este gobierno que durante este año pasado se ha destruido empleo

subidas para crear empleo público

eso es lo que está pasando esto es lo que nos han traído hoy aquí en los tres proyectos de ley incrementar los sueldos de todos los que viven del presupuesto público

y ninguna medida bueno hemos tenido la suerte de que no nos han subido el iva al resto de los mortales eh por ejemplo

no era este el presupuesto que nos habían traído el más inversor de la historia alguna previsión de inversión porque aquí en otras legislaturas sí han venido proyectos de ley urgentes de reforma y queremos esta inversión que no estaba prevista no han traído nada de eso no han traído nada de eso

hay dinero señora corcuera sí claro que hay dinero pero también había más dinero en diciembre

nos traen aquí para subidas de sueldos de empleos públicos

las siguientes y quedan más de cien millónes que no vienen aquí más de ciento cincuenta

más de ciento cincuenta señora corcuera y dónde están en qué se van a gastar

o invertir claro este gobierno viene aquí nos trae tres propuestas

porque sí y dónde están los ciento cincuenta millónes de euros que no vienen en estas propuestas señor lehendakari en qué se van a gastar o invertir

o incrementar los sueldos de quién esto nos falta aquí

pero hay el mismo más dinero que había en diciembre nos están diciendo

o su modelo social y en diciembre cuál era cuál era el modelo social en diciembre del partido nacionalista vasco y del partido socialista ustedes nos trajeron una propuesta de subir la rgi el dos coma veinticinco

ese se supone que era su modelo hace año y medio

a santo de qué viene ahora volver a decir que como sube el salario mínimo ahora hay que subir más la rgi si eso lo acordamos aquí lo votamos aquí sí sí señor consejero a iniciativa suya

y ahora por qué nos dice que como sube la rgi hay como sube el salario mínimo

qué tendrá que ver tampoco nos propone la misma subida ha sido la única excusa que le he oído a usted para decir

el salario mínimo cosa en la que todos estamos de acuerdo que no era bueno

cuál es la única diferencia que ha habido de diciembre aquí para que el gobierno vasco el partido nacionalista vasco y el partido socialista suban la propuesta inicial que tenían y había más dinero señora corcuera

las negociaciones que han tenido durante todo diciembre con bildu para subir básicamente

y nosotros le dijimos al señor consejero que bildu le habrá planteado eso pero nosotros no y que nosotros eso no lo íbamos a votar porque nuestro modelo social

de subvencionados señora corcuera y al señor consejero le dijimos oiga los pensionistas

estamos dispuestos a que se los suba más si quiere que tiene dinero

y se lo votamos a favor ahora los no pensionistas

como los demás como los demás cosa que no han hecho por qué para hacer un guiño como ha dicho el consejero a bildu o a podemos o a los dos porque por lo visto esto iba a tener mucho consenso y dónde está el consenso porque a favor

el consenso debe ser entre los miembros del gobierno porque nosotros estamos actuando en contra y vamos a votar en contra y los demás

este es el consenso el proyecto de consenso que ha traído el gobierno será el consenso dentro del gobierno porque con el resto de la cámara con perdón

nosotros no hemos tenido ninguna actitud obstruccionista señora gorospe es más nosotros nos hemos ofrecido a aprobarle al gobierno estas medidas y votar a favor de las medidas pero claro teníamos que estar de acuerdo

puede aprovechar en un caso los reales decretos leyes

en el que no se enmiende pero es evidente que con lo que estemos de acuerdo votaremos a favor pero con lo que no estamos de acuerdo votaremos en contra

vamos a votar en contra y se lo estoy avisando ya para siguientes troceamientos de leyes por si acaso

a permitir que porque estemos a favor de unas medidas nos cuelen otras que estemos radicalmente en contra y

nosotros estamos en la oposición constructiva por cierto porque les dijimos como les aprobábamos estas medidas no han querido

escucharnos y han tirado para adelante con sus medidas evidentemente

tuvo que retirar su proyecto de ley el segundo

este otro troceado para ver cómo cuela

por lo menos llevó siete reales decretos ley pero ya desde el minuto uno los de los sueldos por un lado y los demás por otros siete llegó a llevar para ver cuáles se aprobaban y cuáles no y quiénes votaban unos y quiénes votaban otros pero esto con los presupuestos con una prórroga

no y por lo tanto como esta medida esta subida de la rgi no tiene absolutamente argumento le he oído a ninguno de los dos grupos explicarme porqué han cambiado su opinión de diciembre a enero

pues evidentemente no nos creemos ninguna de las cosas que están diciendo porque lo único que ha ocurrido fue la negociación con estos señores fue la negociación con estos señores y por eso ustedes han pasado a ese modelo pero es el de estos señores y los modelos comunistoides

tiene que haber rgi sí pero tiene que haber una lanbide que funcione

no somos la comunidad autónoma con menos paro y cómo es posible que tengamos el doble de beneficiarios que andalucía

sin apoyos para sacar adelante sus medidas presupuestarias agobiado por el tiempo y en una situación que les obligaba a moverse pues se les apareció la virgen

bastante laico por cierto pero de un partido que no ya en rebajas sino gratis et amore le dio la luz verde para que aprobara sus propuestas sin modificarlas o sin comprometerse a futuros avances o cambios

de este gobierno no voy a incidir demasiado aunque lo tenía aquí

porque creo que la izquierda estamos perdiendo demasiado tiempo en debates estériles entre nosotros y entre nosotras y creo que es mejor buscar a pesar de las diferencias tácticas puntos de encuentro pero solo voy a decir una cosa a veces si se hace una cosa y luego la contraria lo normal aunque solo sea por estadísticas una de las dos veces es acertar en el caso de elkarrekin podemos

y creo que ha fallado porque además del qué es importante el cuándo y elkarrekin podemos ha sido inflexible cuando tenía que haber sido flexible y ha sido demasiado flexible

una forma de hacer política de este gobierno unilateral que confía en que siempre pase alguien por allí que tenga una necesidad y que le pueda resolver el problema

para suscitar apoyos está esperando que alguien siempre en situación pase por allí y le haga un favor al gobierno guk ez ditugu babestuko lege hauek

qué les pasa a ustedes con las personas más pobres por qué se ensañan con los más pobres por qué inoizko aurrekontu

daukagunean la gente más necesitada tiene que seguir

cómo conjugan record y recortes recaudación record y recortes por qué cuando en otros ámbitos de la intervención pública de la administración pública

por qué se mantienen los recortes a las personas más necesitadas

de los peligros de los populismos xenófobos y luego se abre la puerta a pactar con aquellos que están agitando precisamente el populismo xenófobo con aquellos que trajeron

en términos de querer construir sobre él una alternativa de ultraderecha cómo se puede decir

con el partido popular o con euskal herria bildu cuando hacemos ofertas absolutamente antagónicas e incompatibles cuál es su modelo hacia dónde

su problema es que a la rgi la han dejado sin esencia

de garantía de ingresos y para que los ingresos estén garantizados tienen que estar referenciados algún tipo de indicador que efectivamente

fuera del umbral de la pobreza ustedes retirando esa indexación

pública que no beneficia absolutamente nada ni a la formula ni al modelo ni tampoco a las personas

y se da pie a que se pueda cuestionar una y otra vez el modelo el modelo que sin lugar a dudas y con todos los defectos es un modelo para sentirse orgullosos pero el modelo original

que en esta sociedad vasca los enfermos y las enfermas

la gente tiene derecho a la educación y la gente

y que creo que es madura en términos morales también ha decidido que quiere avanzar

que ustedes hoy han dejado en el ámbito de la subasta y la negociación política cuando debe volver al ámbito de las garantías solidas e inmovibles esa es la oferta que euskal herria bildu sigue manteniendo

al gobierno euskal herria bildu no le ha pedido tiempo al gobierno euskal herria bildu ya le ha dicho al gobierno por qué vía puede transitar para llegar a un acuerdo

esta cuestión euskal herria bildu ya ha hecho su oferta lo que estamos esperando es que el gobierno se mueva porque ustedes creen una y otra vez que pactar es acudir hacia donde ustedes están que pactar es darles el asentimiento a las propuestas que ustedes han hecho eso no es acordar

de la decisión que euskal herria bildu va a tomar también en referencia a los temas que hoy estamos aquí tratando

horrekin topo egiten duelako behin eta berriro pero nosotros no queremos regodearnos en esa debilidad al contrario nosotros estamos aportando una fórmula que

al gobierno pero sobre todo al conjunto del país que es abrirnos siendo la primera fuerza de la oposición a los acuerdos pero esos acuerdos tienen que basarse indudablemente

se tiene que producir un proceso de diálogo y de negociación ez da lehenengo aldia

debate casi diría un tanto rocambolesco sobre los presupuestos

pero este yo creo que ha sido un fracaso de su gobierno usted puede tomar conciencia de su minoría

esta segunda opción no se va a dar nunca nunca en el caso de euskal herria bildu el señor consejero en la última frase de su discurso que creo que él pensará que ya es la última vez que se refiere a los presupuestos del dos mil diecinueve que ya hemos hablado bastante sentirá cierto alivio

habrá que hacer los del dos mil veinte pero es su última frase ha pronunciado la palabra humildad la última frase del último discurso de un procedimiento que ha durado meses

quizás estuviéramos en otras circunstancias quizás hubiéramos tenido un acuerdo entiendan que a euskal herria bildu desde la oposición y desde el liderazgo de la oposición le podría tentar la estrategia de tierra quemada la estrategia de negar el pan y la sal al gobierno y además fuera de poses histriónicas

que daría pie a la confrontación pero no vamos a ir a esa política de tierra quemada vamos a mantener siempre las puertas abiertas pero lógicamente para eso tiene que haber una reciprocidad euskal herria bildu no necesita desesperadamente ni cargos públicos ni colarse en la foto junto al pnv para aparentar cierta centralidad

de ostracismo informativo pero euskal herria bildu sí está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos en base a contenidos desgraciadamente aquí en este procedimiento y en estas tres leyes

callar y votar y eso no lo vamos a hacer de hecho no vamos a votar nos vamos a negar a participar en esta votación como muestra de repulsa a un procedimiento que ha vulnerado el derecho democrático de esta cámara

apretar un botón en la culminación de un proceso de diálogo político democrático

en ese proceso no nos vengan ahora a pedir que hagamos de palmeros eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

sí gracias presidenta vamos a ver señorías del partido popular ustedes rechazaron los presupuestos con un argumento los acuerdos de autogobierno entre el partido nacionalista vasco y euskal herria bildu que nada tenían que ver con las cuentas públicas hoy sabemos además que renuncian a cualquier medida que suponga más solidaridad y más cohesión social

dicen defender hoy todo el mundo sabe en euskadi los vascos y las vascas ya sabemos que no podemos contar con el partido popular cuando las cosas les vayan mal y sobre todo cuando les vayan mal y cuando el gobierno tenga medios económicos sufragar sus problemas el partido popular de euskadi se suma así al partido popular del resto de españa en su decisión de apartarse definitivamente de la política solidaria y adopta una estrategia que es la de sembrar discordia y continuar estigmatizando a los sectores más vulnerables

por qué aquí hay más personas que acuden a las prestaciones señor damborenea de libro porque tenemos desde el dos mil ocho

social que es una ley que salió con el acuerdo mayoritario de esta cámara y que además promueve unas garantías efectivas para los colectivos más vulnerables

a los colectivos que más difícil lo tienen la integración en esta sociedad en lo que es la vida diaria de esta sociedad pues aquí lo tiene la ley nada más y nada menos a usted dice hombre todo el problema que tenemos se debe al gobierno no no se deberá también a que ustedes

los presupuestos para dos mil diecinueve donde habían muchísimas medidas para aplicar en ese sector privado

en euskadi pero ustedes se negaron a esa negociación

con respecto a euskal herria bildu que parece que en democracia esto de no

al tejado más lejano del mundo cómo que no participan en la votación pero qué derecho se ha vulnerado aquí si estamos siguiendo las normas que nos hemos otorgado como propio parlamento estamos siguiendo el reglamento y por lo tanto no hay ninguna vulnerabilidad de ningún derecho

a protestar y a manifestar su posición no acabo de entender eso de que no juego cuando no me gusta lo que se está aquí cociendo decía que en el debate

montescos y capuletos historias de celos y amores no correspondidos
que tenían isiltasuna con el partido nacionalista vasco y parece que ese virus

acordar con el gobierno vasco en su última oferta un total de ciento cuarenta y dos millónes de euros para dos años y con esa negativa más la de este acuerdo que hoy no van refrendar porque ni siquiera

en la votación pues a mí me da la impresión de que ustedes se apuntan a ese club

mejor y puede usted decir que ustedes lo intentan que ya quieren pero mire no

mejor para ustedes ustedes dijeron no a más y mejor empleo

cuando intentaron la negociación con el gobierno vasco la negociación presupuestaria para dos mil diecinueve su prioridad política señor casanova y señores y señoras de bildu su prioridad política está más en dar visibilidad

que en acordar soluciones reales y factibles a las necesidades de la sociedad vasca y lo acabamos de constatar y respecto a la posición de podemos al grupo socialista le cuesta entender que este ejercicio que van a hacer hoy no lo hubieran hecho hace dos meses

cale y se instale en su grupo parlamentario porque descubrirán que se hace más

aunque se vaya más lento de lo que ustedes y a nosotros también nos gustaría que pretendiendo dar saltos para alcanzar los cielos que te hacen a veces caer de bruces

mejoras en la vida de la ciudadanía y sin lograr en definitiva avances

y concluyo los tres proyectos de ley de modificación de la prórroga presupuestaria que estamos debatiendo no son un ejercicio de funambulismo del gobierno

es un ejercicio para los grupos parlamentarios y para los partidos políticos que requiere de altura de miras y de inteligencia política para sacar adelante

que afectan positivamente también a nuestra economía y los socialistas nos mantenemos en nuestra máxima de querer ser una izquierda útil y de utilizar nuestros escaños para la mejora y el avance de las políticas públicas en euskadi y no para dejar abandonado a su suerte a nadie gracias

ha cambiado de sitio usted dice que no ha criticado la fórmula mire

control pasado por presentarla

ustedes acusaron al gobierno de gobernar a trozos

cuando fue la primera un proyecto de ley eh bildu

hace trampas para salirse con la suya exactamente igual decía usted que por qué sube la rgi y que no le habían dado pues porque

lo que ha hecho es escuchar a la oposición en distintas propuestas como a ustedes les escuchó como ahora se está proponiendo en el proyecto de ley eliminar o derogar la disposición adicional sexta de la ley en vigor porque ustedes

se eliminaría eso porque hay más capacidad porque ya no está indexado con el salario mínimo interprofesional y por tanto no existe ese riesgo de que se pueda desincentivar la mano

le han explicado una y otra vez casanova jauna

este es uno de los países más desarrollados del mundo

es uno de los países más desarrollados del mundo y así lo dicen los indicadores sociales y así lo dicen los indicadores

hay un montón que usted conoce a la perfección y hay problemas y a los problemas hay que darles soluciones pero dar solución no es decir que la renta de garantía de ingresos como no es todo lo que yo pido no va a ser nada esa no es la solución la solución de los acuerdos

la vía intermedia para poder seguir avanzando porque eso es una actitud obstruccionista y usted dice esta sociedad es una sociedad que tiene valores

que los pueblos tienen carácter y creo que este pueblo tiene un carácter propio

y que tiene unos valores pero me reconocerá que algo tendrá que ver en esa transmisión de valores el liderazgo institucional en poder

en otras sociedades muy cercanas no existen los mismos valores por qué

en el ámbito del desarrollo humano sostenible no existe en otras sociedades me reconocerá que algo se está haciendo bien para que como usted dice

más avanzados y desarrollados del mundo y para que tenga esos valores algo se habrá hecho bien usted estaba diciendo que es antidemocrático

en el noventa y nueve el señor larreina parlamentario de ea decía que el gobierno había utilizado un instrumento ágil y eficaz para solucionar los problemas de la ciudadanía cómo me puede usted decir que ahora es hurtar el debate democrático cuando entonces

askotan eh bildu los acuerdos que el pnv lleva en cuartos oscuros sin ventanas

acuerdos oscuros en lugares sin ventanas

sintomak el no por el no es algo que está absolutamente rechazado por la sociedad vasca estamos absolutamente convencidos que muchos de ustedes apuestan por la vía efectiva y por la construcción en positivo pero cambien la lógica de eh bildu de esa mesa de los lunes eskerrik asko

señora corcura por recordarle la ley la pactamos nosotros con ustedes

pero le voy a recordar otro hecho porque ustedes estaban en el gobierno y crearon lanbide crearon lanbide malamente y esta cámara tuvo que aprobar una proposición de ley de nuestro grupo para modificar la naturaleza jurídica de lanbide que ustedes habían convertido en un chiringuito

como el mal funcionamiento de lanbide en el control de las ayudas y sobre todo

y es de gestión que empezó con ustedes y por cierto con nuestro voto en contra y bueno el partido nacionalistas vasco a ver yo la verdad es que han hecho ustedes un negocio con sánchez

nos ha ido fantástico menos inversiones destrucción de empleo privado la economía

eso sí recaudamos mucho más batimos el record de recaudación con menos contribuyentes

pero eso pasa aquí en esta comunidad autónoma oiga ustedes que hablan tanto de estabilidad el gobierno ha escuchado a la oposición

a nosotros no les dijimos oiga que no les aprobamos eso de la rgi nos han escuchado

entre lo que propone la oposición pero este gobierno no tiene criterio propio

la propuesta del gobierno es el intermedio de lo que propone el partido popular y lo que propone bildu

si no es tampoco cuestión de cifras y lo saben ustedes que tienen paralizado el proyecto de reforma

y de concepto mire el gobierno ha traído una propuesta

que no tiene su propuesta propia yo pensaba que la propuesta propia del gobierno fue la que trajo en la ley de presupuestos que era el dos coma veinticinco y siguen ustedes sin explicarme porqué

y me habla de la disposición adicional oiga pero si pactamos que la tenían que derogar y trajeron

de nuestra enmienda de totalidad una de ellas de las muchas que pusimos que también había en educación

claro vamos a ver si nos centramos un poco

ustedes están consiguiendo rizar el rizo y el efecto sánchez en aras al consenso que está procurando este gobierno este gobierno trocea las leyes

inédito que haya votos a favor votos en contra abstenciones y no votos claro este es un consenso buscado por el gobierno con tal

que hay que felicitarles porque en fin no solo consiguen trocear los proyectos de ley sino que trocean la cámara absolutamente eso sí sin conseguir
ningún voto a favor eskerrik asko damborenea jauna

ni tampoco se la pudieron colar a la ciudadanía tuvieron que partir la proposición de ley

y tres leyes que es verdad que siguen siendo un pegote de cosas que no creemos que procedan

que se dificulten los acuerdos que también escuchadas algunas cosas que hemos tenido que escuchar acuerdos que por otro lado parece que algunos no tenían ninguna gana de alcanzar

ni hacemos artimañas ni cambalaches ponemos en el centro

y por eso nuestro voto a la propuesta ha sido la de la abstención ez ditugu diskurtso bikoitzak egingo

eta abstentzioa izango da baita ere hurrengo puntuan una abstención porque sabemos que la subida de la ley de la rgi la subida del tres coma cinco por ciento a la rgi en más

es también necesaria y no hay que jugar con eso

nos gusta este proyecto de ley no no nos gusta ni este ni ninguno de los otros dos que vamos a discutir hoy

porque se vacía vacían su propuesta de derechos y esperan que nadie se dé cuenta

en el año dos mil diecisiete decidieron que en lugar de cumplir la ley iban a eliminar la referencia al salario mínimo

no creo que esto sea una casualidad este gran recorte por el que pasan sin mirar

con un veintiocho por ciento menos de lo que la ley les reconoce cobrar una cuantía que sobre el poder adquisitivo de las personas perceptoras es más o menos de unos doscientos noventa euros murrizketa hau

que hace que quien esté en situación de pobreza nunca salga de ella y esto no va de caridad no lo olviden si tenemos herramientas de lucha contra la pobreza deben de luchar de verdad contra un problema que es del conjunto de la sociedad

más o menos buenas o sacarse mejores o peores fotos sino de cumplir la ley y ustedes un año más no están cumpliendo la ley

es muy crítica somos claras y no queremos ni necesitamos marear

que hace que euskadi salga adelante sin dar

en los derechos conquistados por eso proponemos también que aprueben la proposición de ley que registramos el pasado dos de enero para corregir

e ir al fondo de la cuestión demuestren el día que se vote si tan real es la voluntad de hacer crecer este derecho y de preocuparse por la ciudadanía

votando sí a nuestra propuesta eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

evidentemente responde al acuerdo del gobierno de mariano rajoy con los sindicatos por lo tanto estamos a favor tal y como hicimos
y votamos a favor en el congreso de los diputados hace diez días eskerrik asko damborenea jauna

sí gracias presidenta los socialistas vascos intervenimos en este asunto en el turno de explicación de voto porque las razones y los contenidos políticos de los tres proyectos de ley

es qué hacer para que una situación de prórroga presupuestaria

a miles de vascos y vascas cuando contamos con mayores recursos gracias a una acertada y progresiva reforma fiscal y como ya hemos tenido oportunidad de debatir en el punto anterior las razones sobre el contexto en el que se aprueban estas leyes

el voto a este proyecto de ley sobre retribuciones y los socialistas vascos hemos votado a favor

que resulta conveniente y oportuno establecer una serie de medidas destinadas a solventar algunos problemas ocasionados por la prórroga y cuya solución además de urgente es que es inaplazable requiriéndose una norma de rango legal para su aplicación y refiriéndose concretamente

al servicio del sector público además de la actualización de los haberes pasivos y la fijación de la dotación presupuestaria para el parlamento vasco

hemos votado a favor porque el régimen de retribuciones de los funcionarios con carácter general debe sujetarse a la normativa

básico del empleado público y el pasado veintiuno de diciembre señor

y el pasado veintiuno de diciembre por real decreto ley se aprobaron medidas urgentes

públicos este parlamento acordó en mayo del año pasado adoptar iniciativas que posibilitasen una subida generalizada de los salarios en euskadi acorde con las cifras que reflejaban

y los socialistas dijimos entonces y seguimos diciendo ahora que apostamos porque también en el sector privado en el ámbito de la negociación colectiva se produzcan mejoras salariales

ese instrumento necesario para establecer las modificaciones en las condiciones laborales

y simultáneamente señalamos entonces la necesidad ante la responsabilidad pública de las administraciones de propiciar en su propio ámbito de negociación ese escenario en este caso de las retribuciones en los términos que permita la normativa básica estatal con ocasión del debate a la totalidad de los presupuestos de euskadi que ante el nuevo

se fijaban tres líneas de actuación para fortalecer la economía vasca y una de ellas era continuar con la recuperación de crecimiento de los salarios

esencial de la calidad de los servicios públicos y también porque esto supone incentivar las posibilidades de gasto de los empleados públicos

de este mismo año y de los haberes pasivos lo que lleva

millónes casi doscientos millónes de euros en mejora a las retribuciones del personal de la administración general de euskadi de los organismos autónomos de las haurreskolak

de los entes y de las sociedades públicas y de las fundaciones de euskadi mejoran la vida este incremento de retribuciones

sin distinción de ideologías identidades ni sentimientos que al fin y al cabo es un objetivo

en el gobierno por eso estamos en el gobierno para ser útiles en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía vasca

más que en dos mil dieciocho para también acometer ese incremento retributivo hemos respaldado la actualización de las tasas de la hacienda general del país vasco al realizarse de conformidad con el acuerdo que se adoptó en el órgano de coordinación tributaria de euskadi que van a suponer

de ahí nuestro apoyo a este proyecto de ley porque no hemos querido quedarnos en las formas sino entrar a solventar

a las que aumentamos su capacidad económica lo que sin duda va a tener un impacto positivo en la economía vasca

de esta proposición de este proyecto de ley es la subida salarial de las y los trabajadores públicos una subida que es cierto que no es más que la ejecución en euskadi

y los trabajadores al gobierno del estado y que por lo tanto es la mínima subida salarial aceptable para una coalición como la nuestra

sabía perfectamente que nuestro grupo no iba a poner pegas a la subida salarial de las y los empleados públicos y

tal vez precisamente por eso el gobierno vasco decidió utilizar a los trabajadores públicos como auténticos rehenes en una estrategia clara y perversa

el pack diferentes cuestiones para obligarnos a elegir entre aprobar cosas con las que no estábamos

de la no subida de los salarios de las y los trabajadores públicos una estrategia absolutamente

por eso nosotros registramos un proyecto de ley para exclusivamente acometer las subidas

públicas a diferencia de lo que hacía el gobierno eso sí nosotros no incluíamos en esa subida ni a los miembros del gobierno ni a los altos cargos al contrario planteábamos

que en una situación donde no se está trasladando la recuperación económica a la clase trabajadora no nos parece oportuno subir los salarios a los altos cargos como tampoco nos pareció oportuno subirnos los salarios

aclarar porque ha habido una pequeña campaña de mentiras en contra de nuestra coalición nosotros con nuestro voto no se aprobaron los presupuestos presentamos una enmienda para que no hubiera subida de salarios a las y los parlamentarios y fue rechazada pero los salarios de las y los empleados públicos sí nos preocupan finalmente el gobierno decidió retirar el inadmisible pack ante la perspectiva de no sacarlo adelante y ante la perspectiva

de la no subida al propio gobierno no la retiró para negociar

el gobierno no estaba dispuesto a negociar estas cuestiones no queremos nosotros por eso engañar a nadie el gobierno negociarlas o se aprobaban o se rechazaban por lo tanto ante esta proposición de ley concreta para la subida de los salarios de las y los

ha sido la abstención para permitir la subida salarial de las y los trabajadores públicos y para evitar la congelación de sus salarios una vez se ha retirado

y por qué una abstención y no un voto favorable por dos razones fundamentales la primera ya la he comentado porque no estamos de acuerdo

de altos cargos y de gobierno en un momento además donde pensamos que el gobierno

históricos que se han aprobado en el último periodo de crisis y en segundo lugar también porque vemos que el gobierno no está dispuesto a hacer

que se aborde la importante pérdida de poder adquisitivo del funcionariado durante esta última década pérdida de poder adquisitivo que no se compensa con esta subida salarial

con las y los empleados públicos pero por qué una abstención y no un voto en contra

de las mujeres y los hombres que hacen que funcionen los servicios públicos

y ante eso la coalición elkarrekin podemos lo tiene claro en lo que dependa de nosotros mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores

de que no es suficiente pero conscientes de la necesidad que tenían las y los trabajadores públicos de acometer esta subida en estos momentos

bizi kalitatea hobetzeko langileena eta euskadiko ekonomia berpizteko azpiazu defiende subir los salarios para evitar que la economía de un paso

bi mila hemezortzian azpiazu reclama una subida de salarios en euskadi para garantizar el crecimiento gobierno y patronal acercan posturas para que la subida salarial no se limite a la industria

bai bale vamos a intervenir en este turno aunque explicaré luego

empezando por uno de la constitución el veintisiete que dice que todos tienen derecho a la educación se reconoce la libertad de enseñanza

cuatro la enseñanza básica es obligatoria y gratuita el artículo veintiséis de la declaración de derechos humanos que tanto se cita últimamente en esta cámara

instrucción elemental y fundamental y los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

el convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de parís de mil novecientos cincuenta y dos que dice

o el pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo trece la carta social europea

o la carta de los derechos fundamentales de la unión europea pues bien

en este país nuestro

un modelo de educación yo creo que correcto todo es mejorable pero es correcto dentro de ese modelo hay dos variables la pública y la concertada y en el caso de la concertada y mira que durante los dos años anteriores en los pactos que hemos hecho con este gobierno presentamos enmiendas para mejorar la educación concertada y la financiación de la educación concertada

que era otro de los motivos de nuestra enmienda a la totalidad señora gorospe

tiene un problema de infradotación por parte del gobierno sino que este gobierno actúa como si fuera un árbitro

cuando no es árbitro es el responsable es el poder público el que debe garantizar

y obligatoriedad de la enseñanza en el país vasco porque es nuestra competencia exclusiva y esto no está ocurriendo

algún otro grupo el otro día decía tiene que ser gratuita

claro que tiene que ser gratuita pero no lo es y por qué no lo es porque el gobierno vasco la tiene infradotada y yo mire no me hagan mucho caso a mí pero por ejemplo las ikastolas de los cuales son ustedes fervientes defensores les pueden decir

el veintiuno por ciento de la financiación cuando en europa eso no llega al seis o al cinco

el veintiuno cuando tenía que ser gratuita pero es el veintiuno eso está pasando hoy aquí y por qué pasa esto aquí porque antes

por qué está pasando pues porque desde el año dos mil nueve el gobierno vasco

de mantenimiento de gastos fijos de los centros concertados desde el dos mil nueve ni un euro ni la inflación

ni un euro para atender a los inmigrantes en los centros concertados desde hace diez años diez años

sin embargo cuarenta millónes de euros en el presupuesto que venía este año para la pública de cero a tres años solo por eso concepto mientras que a la concertada se le quitaba dinero

y eso es lo que está pasando aquí y cuando el señor consejero nos llamó para las medidas estas urgentes que iban a venir

le dijimos oiga por qué sube usted la rgi al tres coma cinco cuando su propuesta era el dos coma veinticinco oiga y por qué siguen congelados los módulos

porque nos parece muy bien que traigan ahora que se pueda subir el sueldo de los maestros y maestras de la concertada pero esto no arregla nada

y la señora consejera lo sabe perfectamente porque los maestros de la concertada salvo los de las ikastolas

pero el resto no porque ela no firma el convenio y como esta ley mismo dice que este es el máximo que se podrá abonar según el convenio colectivo

y esto viene en la ley se pone en manos por parte del gobierno de un sindicato sí sí para que sea el que decida cuándo y cómo se sube

y mientras tanto pero esto es en cuanto a los sueldo de los funcionarios por eso le digo que esto no arregla nada pero segundo lo que no arregla para nada

completo de la educación concertada y nosotros ayer pedimos un gesto

no se ha reflejado nada de lo que nosotros planteamos

y el gesto que nos ha hecho el consejero hoy ha sido tan tibio tan tibio que nos vamos a quedar en la abstención porque claro es decir este gobierno se compromete a modificar y a elevar los módulos de gastos fijos de la concertada

si nos dicen que sí votaremos que sí cambiaremos el voto pero si nos dicen que seguiremos trabajando

porque así estamos como estamos y repito que es un derecho fundamental y gratuito debe ser gratuito y para eso

la administración competente en esta comunidad y estamos hablando de la mitad de los alumnos de esta comunidad

y los padres que llevan esos alumnos pagan impuestos y como pagan impuestos tienen derecho

gratuita cosa que no está ocurriendo

pero qué medida trae también de sueldos de sueldos que dependen de la administración pública de sueldos que dependen de este gobierno

la infradotación presupuestaria que tiene la educación concertada y aquí y este sí que es un derecho fundamental que viene en todos los pactos internacionales y viene como se lo he leído

es que deje de trabajar tanto en cosas que no llegan a ningún sitio y en vez de trabajar tanto suban los módulos señora consejera verá que rápido se arregla sí

la publica en cuarenta millónes este año es la mitad del alumnado en la enseñanza cero tres años

y qué pasa con la concertada cero no cero no le quita uno millón

esto es lo que tenemos hoy aquí por eso era mejor

anterior que no quitaba que era la propuesta de este año del gobierno y por eso repito nos vamos a abstener porque entendemos que el señor consejero ha tenido bien un gesto pero lo consideramos insuficiente para que nos creamos que de verdad

que es su responsabilidad como gobernantes y estamos hablando de un derecho fundamental del cincuenta por ciento de los estudiantes de este país especialmente

en materia educativa obedece al mismo criterio general seguido en los puntos debatidos con anterioridad y que no es más ni menos que intentar que la prórroga presupuestaria suponga el menor perjuicio posible a la ciudadanía vasca

pero que se ha mostrado eficaz más justa y más progresiva además en este caso los socialistas vascos
mesedez isiltasuna mesedez si es que no me da la voz

gracias presidenta además en este caso los socialistas vascos hemos apoyado un proyecto de ley que fija la dotación presupuestaria para la universidad del país vasco y en concreto una dotación adicional

de los conciertos por un importe de diecinueve millónes de euros casi veinte consideramos que la universidad pública vasca

a los nuevos retos para profundizar en las políticas académicas e investigadoras para mejorar sus infraestructuras y para estar a la altura de otras ofertas universitarias que se presentan en el entorno algo que se nos viene reclamando de forma continuada desde las autoridades de la propia universidad del país vasco hasta los docentes

los socialistas hemos votado a favor de la actualización de los componentes de personal de los módulos de los centros educativos concertados que ya estaba prevista en el proyecto de presupuestos para dos mil diecinueve porque de esta forma se incrementan en el mismo porcentaje establecido para las retribuciones del personal de los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria es decir se incrementa el dos coma veinticinco por ciento aplicándose dicha actualización

los socialistas vascos defendemos un nuevo pacto educativo que tenga como eje la escuela pública que adapte la actual ley desde el consenso entre los agentes educativos porque es de verdad la única garantía de perdurabilidad son esos consensos los que también explican por qué hemos hablado de la enseñanza concertada y el porqué de su peso en el sistema educativo vasco

reivindicaciones laborales legítimas del personal docente de la enseñanza concertada reivindicaciones que deben resolverse en el ámbito de la negociación colectiva a la administración le corresponde la máxima exigencia en hacer valer las condiciones de los conciertos pero nunca

entre la patronal y los trabajadores y concluyo los socialistas vascos hemos apoyado este proyecto de ley en materia educativa cumpliendo hoy con la responsabilidad de garantizar la actualización de los módulos educativos porque evitamos así perjuicios de una estricta aplicación de la prórroga presupuestaria vigente una prórroga

para el gobierno y para la ciudadanía vasca en general comparada con los presupuestos que se trajeron aquí en el mes de diciembre que eran unos presupuestos y unas cuentas públicas mejor adaptadas a la realidad de euskadi para este año

hoy con los tres proyectos de ley que hemos aprobado se avanzan en algunas mejoras sobre la propuesta de prórroga presupuestaria y se decía hace un tiempo una prórroga presupuestaria efectivamente no es un drama

sí es un obstáculo para lograr un mayor avance social en las circunstancias económicas más favorables que hemos tenido después de la crisis económica
que hemos pasado nada más y gracias eskerrik asko corcuera anderea

hoy el debate se fija en el coste de oportunidad que suponía el sentido del voto de esta iniciativa el dilema de decidir entre los cañones o la mantequilla el gobierno vasco ha decidido emplear más recursos en cañones que protejan su modelo de educación segregador y privatizador

no ha querido invertir en los recursos para blindar un modelo de educación pública y de calidad para toda la ciudadanía sin duda elkarrekin podemos defiende de forma contundente los intereses de los y las trabajadoras de la enseñanza concertada

a la huelga sin que esto suponga que entendemos también el enfado de las personas usuarias

es decir familias y alumnado pero este problema no es lo que debatimos hoy aunque muy interesadamente quieren hacerlo ver así

la patronal de la enseñanza de iniciativa social una patronal que está sujeta al mismo concierto económico

que ya renovó las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras es gobierno vasco con su apuesta clara por la red concertada

los responsables de esta situación de bloqueo y de no ofrecer soluciones

hoy elkarrekin podemos con su voto ha apostado por la mantequilla ha apostado por una educación pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco

sí a una escuela pública innovadora que esté adaptada a las necesidades del siglo veintiuno tanto a nivel metodológico como organizativo hoy hemos apostado por una educación pública e inclusiva una escuela para todos y todas y que no solo integre sino que incluya una educación participativa y co creada que cuente con la aplicación de toda la comunidad educativa hoy hemos votado

porque no podemos permitir que las escuelas vascas sean el reflejo de las desigualdades sociales porque disfrutar de una educación de calidad es un derecho

deben tener a su alcance independientemente de su estrato social su nivel económico su edad su residencia u origen hoy elkarrekin podemos

en igualdad de oportunidades hoy elkarrekin podemos ha dicho sí al derecho a la educación obligatoria y gratuita al derecho a la educación para todas las personas independientemente de su nivel económico porque la educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo vasco porque la educación pública es la única opción que garantiza la cohesión social porque euskadi necesita un modelo de país moderno que esté a la altura de los retos del siglo veintiuno con un sistema educativo público

e inclusivo los niños y niñas de hoy lo agradecerán pero sobre todo lo agradecerán los adultos del mañana mila esker

sin avergonzarnos sin complejos con naturalidad sin mirar de reojo a ver lo que dirán o dejarán de decir en definitiva por convicción

por responsabilidad hemos votado sí porque creemos en el sistema educativo vasco como un conjunto como un sistema integral que garantiza el bien público que es la educación con el pleno convencimiento de que en euskadi no tenemos redes educativas subsidiarias

llamar la atención con este punto que nos parece fundamental después de estos tres intensos puntos de la mañana

inclusiva cuando este colectivo presentó las firmas cumplió los requisitos y luego posteriormente este pleno con los votos de tres partidos rechazaron la iniciativa esto supuso que los proponentes las proponentes tuvieran que sufragar el costo de la iniciativa legislativa popular los gastos de la misma y que por tanto

alguno de los problemas o imperfecciones que podía tener la actual ley que regula las iniciativas legislativas populares

deja en manos del debate parlamentario del debate en esta cámara y no de la legislación de lo que le gusta a un partido a otro y no de la legislación lo que pasa con los gastos en concreto de una iniciativa legislativa popular

cuando hablamos de arbitrariedad en la decisión de un pleno para poder cobrar los gastos

y que sean respetuosas con los derechos humanos que en nuestra opinión son las dos líneas que tienen que marcar la tramitación parlamentaria y la compensación de los gastos de una iniciativa legislativa popular uno

del procedimiento y que sean evidentemente respetuosas con los derechos humanos pensamos que en ese caso se tienen que tramitar otra cosa es luego el sentido

pensamos que la ley que regula las iniciativas legislativas populares puede y debe modificarse puede avanzar puede corregir errores imperfecciones olvidos

y nosotros lo reconocemos se hizo además y cito textualmente para facilitar que la ciudadanía y los grupos sociales puedan tomar parte en la función legislativa haciendo más sencillo y menos restrictivo que puedan proponer iniciativas que luego sean debatidas en el parlamento pero vuelvo a decir

quizás lo empeoró esa ley de dos mil dieciséis buscaba facilitar y buscaba

para tramitar una ilp pero pensamos que

lo que decía es que los gastos realizados por la comisión promotora en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas serán resarcidos cuando reuniendo los requisitos exigidos en esta ley haya alcanzado la publicación en el boletín oficial del parlamento vasco

lo que viene recogido es que los gastos realizados por la comisión promotora

serán resarcidos con cargo a los presupuestos del parlamento vasco cuando reuniendo los requisitos exigidos de esta ley haya sido tomada en consideración por el pleno de la cámara y luego señala el importe máximo que ahí no discutimos si tiene que ser más

euros en nuestra opinión con la nueva redacción la compensación por los gastos realizados pasa a depender de la concurrencia objetivos es decir cumplimiento de la ley del procedimiento y de la tramitación está sujeta a una valoración meramente política y en este sentido arbitraria es lo que ponemos en cuestión de la valoración que ha hecho

proposición de ley zentzu horretan esaten dugu

edo kontra la iniciativa legislativa popular es una herramienta y además esto también

para la ciudadanía para la ciudadanía que quiere proponer cosas al parlamento que no

cualquier grupo no ha tenido la idea de presentarlo para regular nuevas realidades sociales que no hemos abordado como decía

que en el parlamento no se han abordado por eso desde elkarrekin podemos establecer una barrera de índole económica en este caso la compensación por los gastos realizados vuelvo a decir cuyo abono no depende de criterios objetivos de criterios meramente técnicos y legales sino de criterios políticos

no depende de criterios previsibles y dotados de seguridad jurídica los impulsores de las iniciativas legislativas sino que dependen de siempre

que queremos quitar por tanto lo que proponemos en el día de hoy con ese objetivo de corregir retrocesos impedimentos

proponemos modificar tres cuestiones concretas de esa ley de dos mil dieciséis el primero declarar la gratuidad de los pliegos o formularios

respecto al requisito para la compensación por los gastos realizados recuperar el sentido original de la ley de mil novecientos ochenta y seis por entender que es el más fiel al espíritu democrático y participativo incluido también en la exposición de motivos de la ley de dos mil dieciséis es decir que sean

popular los gastos sean asumidos por el presupuesto del parlamento vasco y en tercer lugar una cosa tan concreta como delimitar el marco temporal de la presente reforma

dute kostu guztia legebiltzar hau tramitazioaren kontra bozkatu duelako y aprovecho en este momento también para

de la escuela inclusiva al señor sabin zubiri presentante de esa iniciativa legislativa popular en esta cámara él acababa al final de su discurso

nacida del debate sobre la necesidad de la inclusividad en la escuela pública

ciudadana en esta institución parlamentaria y decía para reflexionar aunque en general animamos a

nuestra experiencia francamente visto lo anunciado pues diríamos

particulares que se organizaban voluntariamente también hay que decirlo pero que también asumían un riesgo porque este parlamento una vez que

compensa esos gastos si no se tramita esa ley que ese riesgo desaparezca

que no se repita ese es nuestro deseo que las iniciativas legislativas populares sean lo más sencillas que no simples accesibles y que participar merezca también el esfuerzo y

negativas que las iniciativas legislativas populares puedan ser debatidas y tomadas en cuenta como una oportunidad que nos pide la ciudadanía a la que no debemos negarnos por acordar unos mínimos

señoras consejeras señor consejero bien estamos ante la iniciativa que ha presentado el grupo podemos en relación con la reforma de la regulación de la iniciativa legislativa popular y nosotros tenemos que decir que

legislativa popular es un instrumento muy importante y por ello hay que regularla con mucho rigor con garantías

que será la aceptación la tramitación o el rechazo por parte de esta cámara en relación con las competencias que tiene desde luego legislativas

fue muy constructiva e interesante la tramitación

legislatura de la proposición de ley impulsada por el grupo mixto por el señor maneiro en relación con la actualización de todo

a las condiciones a los tramites que componen la iniciativa legislativa popular la ley diez barra dos mil dieciséis de treinta de junio facilitó a la ciudadanía y a los grupo sociales también usted lo ha recordado el tomar parte en la función legislativa

tramites más sencillos menos restrictivos la posibilidad de proponer iniciativas para su debate en el parlamento vasco

se canalizaba de una manera más posibilista y eso era algo que

por una amplia mayoría o algunas cuestiones no quedaron perfectamente acordadas pero podemos hablar

en lo que fue el avance en la actualización de la ley de iniciativa legislativa popular y desde luego y a partir de ahí y visto lo que hicimos en ese trámite

legislativo hace tres años tengo que decirle que mi grupo está conforme actualmente con lo regulado en esa ley

legislatura y entiende que no hace falta cambiar las condiciones de puesta en práctica de la iniciativa ni en lo relativo

ni tampoco en lo relativo a la compensación de los gastos realizados y en consecuencia tampoco a la cuestión temporal de la que usted hacía referencia mi grupo está de acuerdo con la regulación

que se contiene en la ley diez barra dos mil dieciséis y por ello entiende que en este momento no es necesaria

es lógico además que la iniciativa legislativa popular que la iniciativa popular deba de confirmarse deba de contrastarse con la capacidad legislativa que tiene en exclusiva el parlamento y por ello la toma en consideración de la proposición de ley en la iniciativa contenida tiene como trámite obligatorio además

su toma en consideración por órgano legislativo en pleno en su capacidad fundamental para surtir efectos e instalarse en el trámite legislativo

hay que asegurar la seguridad jurídica hay que asegurar las garantías y las condiciones legales y eso lo da un acomodo a un trámite de esas características que surte efecto además

fue una ley de avance en la participación ciudadana y por un amplio y mayoritario y cualitativo acuerdo que hemos referenciado se rebajó el número firmas necesarias se simplificaron trámites requisitos condiciones se aumentó la compensación se amplió el protagonismo y la presencia de los proponentes en la tramitación de la iniciativa en los pasos

es decir la cuestión quedo bien y bien está regulada desde nuestro punto de vista desde nuestro punto de vista también el planteamiento

puede tratar de impulsar el de la improvisación

el de la ligereza o el de la creación de estructuras paralelas de iniciativa popular sin rigor y garantías necesarias

corre riesgos y eso nosotros tenemos que analizarlo así de una manera sensata a usted le parecerá rigurosa pero

sus posibilidades de éxito como tiene sus posibilidades de ser rechazada en relación

la soberanía popular decide que es el trámite fundamental en la toma en consideración o sea que

como lo hace y como la que tiene el gobierno vasco o como la que tienen los grupos parlamentarios

desde nuestro punto de vista trámites como el análisis por parte de la mesa del parlamento vasco sobre todo lo que tiene que ver con las garantías que tiene el texto o la iniciativa para su publicación pero también la toma en consideración porque es a partir de ahí donde

los trámites que establecimos en la ley diez barra dos mil dieciséis como un avance y como una garantía entendemos que en ese sentido no es necesaria

fue un avance está bien regulada y votaremos en contra de la

vamos a votar en contra por coherencia por coherencia personal ya que junto a los señores maneiro de upyd que fue el proponente

barrio del grupo popular y la señora otadui un servidor formó parte de aquella ponencia que durante casi tres años de la pasada legislatura trabajamos para buscar y alcanzar los mayores y mejores acuerdos y consensos en una ley que hiciese más fácil a la ciudadanía y a los grupos sociales

y lógicamente por coherencia política ya que los mencionados no integrábamos la ponencia a título personal sino que representábamos

upyd seguimos presentes en esta cámara también vamos a votar en contra por seriedad y por responsabilidad

a la evolución de la sociedad pero no nos parece ni serio ni responsable plantear una modificación legal

después de su aprobación prácticamente por unanimidad sin ningún hecho objetivo nuevo

entiendo que su grupo señor martínez no estaba presente la pasada legislatura y por tanto no intervino en la elaboración de esta ley pero los que sí estábamos

y aprobado y también vamos a votar en contra por respeto al trabajo parlamentario

político por otros lares es de destacar y poner en valor el que los cinco grupos que formamos esta cámara la pasada legislatura tan distintos y dispares pero que representábamos a la sociedad vasca llegásemos a un entendimiento y a un acuerdo casi total en el articulado de esta ley y esto creemos que merece un respeto aunque había planteamientos distintos en muchas cuestiones

se buscó el equilibrio y el acuerdo entre diferentes y se alcanzó la unanimidad en casi todas ellas un acuerdo amplio de esos

y cuál es su error garrafal de base señor martínez sobre el que además justifica su iniciativa iniciativa por cierto política

nos comenta que se modifican con la nueva ley se modifican las condiciones para la compensación de gastos realizados y esto señor martínez es radicalmente falso ya que no ha habido ninguna modificación

son exactamente las mismas que se aplicaban con la anterior ley del ochenta y seis dice también que con la nueva redacción la compensación por los gastos realizados pasa de depender de la concurrencia de unos hechos objetivos a estar sujeta

cuando menos resulta curioso y llamativo que una iniciativa presentada por un grupo parlamentario achaque a las decisiones adoptadas por el pleno de la cámara a la que pertenece

meramente política y en este sentido arbitraria y considere que ello resta calidad democrática las decisiones del mismo

elkarrekin podemos va a votar siempre favorablemente a la toma en consideración de todas las iniciativas legislativas populares que se presenten en esta cámara

hablando de calidad democrática y de respeto de pluralidad sí que creo interesante hacer una breve referencia breve no se asusten a la tramitación de la ley ya que ustedes por deferencia no estaban y puede ser interesante también refrescar la memoria a todos y a todas

para reformar la ley de mil novecientos ochenta y seis aunque finalmente en aras a la claridad normativa se aprobó una ley nueva

la proposición de ley recogía una actualización de las cantidades máximas de compensación

y también planteaba la posibilidad de un anticipo no superior a dos mil euros para afrontar los primeros gastos de recogida de firmas abierto el plazo de enmiendas se presentaron un total de cuarenta y cuatro enmiendas de las que finalmente solo se reservaron dos para el pleno final una del partido popular del señor barrio referente al artículo uno de eh bildu del señor lópez de munain referida al artículo dos las materias excluidas de ilp en relación al tema que usted plantea hoy recogido

una de los nacionalistas vascos otra de los socialistas vascos y otra del grupo popular

y ninguna de ellas de estas tres enmiendas planteaba modificaciones en el sentido que usted interesa con su proposición de ley

con la asistencia de todos los ponentes de los grupos parlamentarios por eh bildu socialistas vascos y upyd el texto original de la proposición sumándose el grupo popular también a lo recogido en el apartado tres relativo al anticipo

del cinco de junio del dos mil quince el que finalmente se convirtió en artículo catorce compensación por los gastos realizados en sus tres apartados fue aprobado por unanimidad

de dos mil quince los servicios jurídicos de la cámara elaboraron unas notas sobre el mismo que con fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince fueron trasladadas a los grupos y un periodo amplio de reflexión y debate unos seis meses principalmente en lo relativo al artículo once la participación

se llegó a un amplio consenso y equilibrio en los planteamientos de los ponentes siendo aprobada

también le voy hablar utilizando su terminología de los obstáculos retrocesos e impedimentos

entendiendo que el requisito numérico era uno y es uno de los elementos más importantes de la regulación de esta figura se redujo la cifra

estableciéndose así unos de los porcentajes más bajos en españa el cero coma cincuenta y seis por ciento

es esto un obstáculo o un retroceso señor martínez se ampliaron las personas que podían firmar una ilp no solo las inscritas en el censo electoral vasco sino cualquier persona

siempre que pertenezca a algún estado de la unión europea o resida legalmente en euskadi

se permitía el uso de las nuevas tecnologías con la posibilidad de la firma electrónica en páginas web es esto

un retroceso o un obstáculo señor martínez se estableció que los promotores tuvieran voz durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa de hecho como hemos visto recientemente el debate parlamentario se inicia con la defensa en pleno de la iniciativa por parte de una persona representante de la comisión promotora es esto un obstáculo o un retroceso señor martínez

la disposición adicional primera dice que al comienzo del proceso de recogida de firmas esto se introdujo a iniciativa de eh bildu

se habilitarán dentro de las disponibilidades municipales y en los términos autorizados por el ayuntamiento competente locales para que aquella desarrolle sus funciones legales

y se incrementa en un cincuenta por ciento la cantidad por compensación de los gastos realizados pasando de doce mil a dieciocho mil euros es esto un obstáculo o un retroceso todos estos y alguno más

son los obstáculos retrocesos e impedimentos que tiene la ley diez barra dos mil dieciséis frente a la anterior de mil novecientos ochenta y seis

importantes avances en esta materia al minimizar las principales dificultades planteadas para su uso que eran básicamente

de firmas y los trámites burocráticos y que no es cierto lo que usted utiliza como justificación para su iniciativa ya que no ha habido ningún retroceso en la materia de compensación de gastos más bien al contrario un incremento del cincuenta por ciento de las cantidades máximas a percibir

la posibilidad de dar un anticipo de hasta dos mil euros para los primeros gastos de recogida de firmas

que con la nueva ley se había producido un retroceso en esta materia ya que eso

la ilp de la escuela inclusiva decía que son para propuestas que en parlamento no se han abordado no voy a entrar en esa materia pero

la ley dice que se dieron cuenta de que si no se tomaba en consideración en esta cámara

la ley fue publicada en el boletín oficial del estado el día veintiuno de julio del dos mil dieciséis

en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas serán resarcidos con cargo en los presupuestos del parlamento vasco cuando

haya sido tomada en consideración por el pleno de la cámara y por importe máximo

el error la equivocación yo creo que está bien claro de hecho está más claro que la ley anterior que es lo que se pretendió y por otro lado entendemos

poco más de dos años ni el número de iniciativas legislativas populares registradas

permiten hacer una evaluación objetiva de la nueva ley para ver si se han cumplido o no los objetivos que perseguía su aprobación de hecho

que una de ellas a la que usted se refería sí se ha beneficiado de la rebaja del número de firma creo que fueron más de diecisiete mil con la ley anterior se exigían treinta mil amaitzeko

menos mal que no hemos propuesto una reforma completa de la ley que ha sido bastante concreto lo que hemos hecho mis disculpas a los de la anterior legislatura mis disculpas por hacer una iniciativa a ver al señor barrio para explicar lo que

dice nuestra iniciativa nuestra iniciativa lo que dice es que una vez los requisitos cumplidos es un previo a la recogida de firmas

lleva todo el proceso nosotros es después cuando viene aquí al debate parlamentario es cuando décimos que si se han cumplido los requisitos anteriores se han recogido las firmas como se tienen que recoger se ha cumplido

sea gratuito y además sería una mejora que por una vez cuando suelen traer ejemplos de algún otro sitio en este caso del congreso

de la ley que regula esto en el congreso de los diputados por último se establece una compensación estatal por los gastos realizados siempre y cuando se alcance el número de firmas

en la vida pública recogida en la constitución eso es lo que queremos traer aquí que una vez que se haya cumplido todos los requisitos que tengamos todas las firmas recogidas eso se pueda compensar

opinará una cosa o la contraria se tramitará o no se tramitará pero nosotros lo que estamos diciendo es muy muy muy claro

creo que la intervención inicial se la esperaba de otra manera porque otra cosa no pero mezclar y embarrar ha hecho usted

por la mañana respondiendo a mi portavoz parlamentario sí

para nada en ningún sitio nos podemos juntar mañana y repasar el diario de sesiones de nuevos obstáculos no he hablado de eso he hablado de que la ley mejoraba

y eso lo décimos lo único que estamos diciendo es que en el tema de los gastos pues bueno

puede ser un descuido puede ser que no había acuerdo en ese tema pero a mí personas que han estado en esta tramitación parlamentaria que evidentemente no voy a citar porque no ha sido un debate público también me ha dicho pues bueno esto podía haber sido un tema que podíamos haber abordado

ningún momento ni estoy cuestionando el trabajo de dos mil dieciséis ni es más legítimo el del dos mil dieciséis ni es más legítimo el mío en este momento no hay cuestión de legitimidad ahí pues mis felicitaciones y fue por unanimidad yo no estaba mi grupo no estaba

en esa en esa cámara y sobre cuando se da alguien cuenta

ni mi grupo parlamentario ni los tres partidos que forma mi grupo parlamentario son perfectos yo sé que usted que viene del pnv

eso lo sabemos todos nos lo enseñan desde pequeños en la televisión pública vasca eso es lo que nos enseñan yo voy aprendiendo día a día

periodo corto que llevo como parlamentario voy aprendiendo

yo reconozco que yo y mi grupo se dio cuenta de que se podía mejorar le ley después de ese debate lo reconozco que conste en acta no sé qué tiene de malo

no venir aquí con toda la lección sabida yo creo que la autocomplacencia a veces

mala compañera y mal compañero de viaje mala compañera lo que estamos diciendo lo único que estamos diciendo y no hagamos demagogia es que si se cumple la legislación que si se cumplen los requisitos los gastos se compensen por qué el grupo parlamentario elkarrekin podemos el de euskal herria bildu el del partido popular el del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi

pueden proponer proposiciones de ley que sean admitidas a trámite o no

a los grupos y a los parlamentarios y a los asesores lo único que estamos diciendo

no se compute a la ciudadanía que se quiere organizar para traer iniciativas a este parlamento solo eso no estamos hablando de otra cosa centremos el debate y por último me ha hecho una pregunta sí votaremos a favor de todas las iniciativas legislativas populares que cumplan

humanos todas las iniciativas legislativas populares que vayan en contra de los derechos humanos evidentemente no contarán
con nuestro voto y ya saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo gracias eskerrik asko

perfectamente y he entendido perfectamente su iniciativa pero ya le he dicho y le vuelvo a decir que no estamos de acuerdo

de alguna manera descalifica algo tan importante como es el pleno del parlamento en relación con

de una iniciativa legislativa popular es perfectamente establecido en la ley diez barra dos mil dieciséis y que tiene que llevarse a cabo no solamente la valoración de la mesa del parlamento vasco que es una valoración objetiva de trámites formales sino la valoración política

que además se va a instalar en el trámite legislativo yo creo que esa es la seriedad eso es el rigor

en consideración sean los mejores para la ciudadanía sea la búsqueda de firmas la búsqueda de elementos políticos la búsqueda de elementos argumentales la búsqueda de elementos jurídicos que convenzan a esta cámara y ese es el elemento fundamental eso también es un reto eso también hay que hacerlo bien y no

con falta de garantías que puedan utilizar el resquicio que el señor martínez les permitía en aquel momento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zorrilla jauna zurea da hitza

y podremos ver que en ningún caso ha dicho que la ley mejoraba

quizás no haya dicho hoy aquí en este estrado en este

dice que supone de facto un obstáculo injusto y

sí yo no sé si le ha quedado claro o no le ha quedado claro que con la nueva ley no se modifican las circunstancias de la ley anterior

de la proposición de ley no ha querido entrar en ese tema y por si acaso le ha quedado duda pues aparte de lo que decía la ley ocho barra mil novecientos ochenta y seis

hay una resolución general de la presidencia de trece de febrero del noventa y ocho señor martínez creo que es importante y que

julián orella barrios actualmente pertenece a su grupo o no

que para el resarcimiento de los gastos año mil novecientos noventa y ocho para el resarcimiento de los gastos originados por una iniciativa legislativa popular

se establezca será preciso primero que la proposición de ley haya sido tomada en consideración por la cámara y publicada en el boletín oficial del parlamento vasco

que la comisión promotora justifique en forma los gastos ante la mesa

será la determinante para fijar la cuantía por tanto no hay ninguna modificación

a la del dos mil dieciséis en estas condiciones salvo que se incrementa en un cincuenta por ciento la cuantía máxima para recibir en caso de ser subvencionado y contemplar el anticipo de los dos mil euros para la recogida de las primeras firmas decía que una persona de la ponencia

quiénes somos por tanto dice que podría haberlo hecho mejor pues el bajo su conciencia nosotros creo yo puedo hablar por mí creo que el

pero los que estuvimos intentamos hacer la mejor ley posible buscando todos los equilibrios posibles le he hecho una pregunta

y me ha dicho que ustedes espero recordársela como decía el otro día como decía ayer aitor esteban le perseguirá por toda europa aquí le va a perseguir en este parlamento

dicen que van a votar siempre favorablemente a la toma en consideración de todas las iniciativas legislativas populares que se presenten en esta cámara pues muy bien lo leeremos una y otra vez siempre que cumplan los requisitos

ejemplo dos ejemplos solo le voy a poner dos ejemplos basta que ha entrado a ello le voy a poner dos ejemplos la pasada legislatura señora presidenta

una iniciativa legislativa popular para la modificación de la rgi liderada por el señor maroto que a pesar de contar con los avales legalmente exigidos treinta mil firmas fue rechazada por todos los grupos parlamentarios

que si ustedes hubieran estado aquí también hubieran votado en contra pero por lo que me dice

tendrán que votar a favor porque cumple los requisitos treinta mil firmas en aquel momento que eran los requisitos legales y en este
caso del planteamiento isiltasuna mesedez le aclaráis luego una vez de que acaba

también tienen derecho a la compensación de gastos con dinero público iniciativas que son rechazadas por esta cámara de manera unánime y el otro ejemplo

le quiero recordar que aquí hubo una ilp de kidetza para regular

sabe quién fue el único parlamentario que votó en contra de esa toma en consideración el día veintiocho de junio del dos mil doce el parlamentario de izquierda el parlamentario de izquierda unida votó en contra de que se iniciase que se tomase en consideración con una decisión arbitraria y política por supuesto

todos los demás apoyaron esa iniciativa y se tramitó como le decía antes la ley diez barra dos mil dieciséis fue la última aprobada en la pasada legislatura y yo me imaginaba que los grupos que

aunque no estaban en el parlamento y no tenía ninguna duda de que de haber seguido la actividad parlamentaria al menos la producción legislativa del parlamento en algunos casos incluso se achacaba que escasa con más razón y en este sentido

tras las elecciones del veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis en la toma de posesión

ya nos ha dicho y ya me había dado cuenta de que la iniciativa se presentó justo al día siguiente de que aquí fue rechazada la ilp para la escuela inclusiva avalada por más de diecisiete mil firmas y presentada por el ciudadano sabin zubiri

pero sí que esto unido a la retroactividad que plantean para que se incluya esa iniciativa

algo pudiera tener que ver con la adscripción política de este ciudadano parece que ahora vamos a legislar para casos concretos

para la generalidad de los casos no para los casos concretos y esto tiene calificativos pero yo no los voy a utilizar simplemente para terminar frente a una legislación a salto de mata

y seria aprobada con el mayor consenso posible y con vocación de permanencia en el tiempo garantizando la seguridad jurídica besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

el grupo socialista como se ha podido ver ha votado favorablemente

porque desde el grupo socialista fundamentalmente creemos en la participación y porque somos conscientes de que la ley que aprobamos en la pasada legislatura

sí quedaron cuestiones por atender ahora bien también le digo señor martínez zatón que no compartimos las propuestas concretas que nos proponen

le han contado pero yo se lo voy a recordar que en dos mil dieciséis se produjo la aprobación de esta ley que regula la iniciativa legislativa popular una aprobación

un amplio consenso porque todos los grupos fueron capaces de ceder posiciones para lograr avances significativos con respecto a la legislación que hasta entonces estaba vigente

que estaba basada tal y como usted dice en su exposición de motivos no sino en la ley

en todos los asuntos que les conciernen es una reforma que se lo han recordado con mucha vehemencia y con mucho mayor tiempo que el que yo voy a tener aquí que facilitó

presentar iniciativas para que fueran debatidas en este parlamento las más importantes pero no las únicas aunque algunas ya lo han mencionado se rebajó el número de firmas de treinta mil se abrió el espectro de personas que podían firmar y que los promotores pudieran participar durante toda la tramitación

todas estas modificaciones se hicieron con ese objetivo claro señor martínez y nosotros creemos que ese objetivo se ha cumplido por ello no podemos

y un impedimento para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular fundamentalmente porque esa afirmación y lo sabe usted

ahora bien usted nos plantea la necesidad de volver a debatir y para nosotros volver a debatir nunca es

creemos que con una visión excesivamente reducida del objetivo que ustedes nos proponen porque creo que solo lo hacen desde un punto de vista economicista de reembolso económico de gastos nos plantean solamente que debatamos sobre cómo y cuándo se reembolsan los gastos

o puede generar a los promotores de iniciativas y yo creo que es bueno que recordemos que quedaron otras cuestiones pendientes en aquella tramitación por ejemplo y es algo que se mencionó aunque el señor zorrilla no ha querido hacerlo en su intervención

el proceso de recogida de firmas electrónicas se mencionaba la posibilidad de que irekia pudiera tener un espacio para facilitar esa recogida de firmas si lo miramos desde la perspectiva economicista que ustedes nos han planteado yo creo que es mejor buscar otra forma de remover esos obstáculos que el simple fírmese un cheque en cualquier caso

centrar el debate de esta ley en un tema exclusivamente económico yo se lo he trasladado de forma previa de cuánto cuándo

sino que creemos que sobre las experiencias recientes que hemos tenido en esta cámara que han sido

debatamos sobre cómo podemos facilitar o mejorar aún más la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas por ejemplo a través de los medios electrónicos

sesgadas un poco la relación de gastos que se nos han presentado hemos visto que parte de ellos tienen que ver con esa tramitación electrónica y no con cualquier otra cosa y eso

fácilmente sin necesidad de abrir una modificación de la ilp por tanto nosotros lo que creemos es que desde la seriedad desde la responsabilidad desde la coherencia creo que nosotros vamos a ser capaces sin miedos y sin prejuicios de volver a abrir un debate

amplio en esta cámara para mejorar esa herramienta que para nosotros es tan potente de participación ciudadana como es la iniciativa legislativa popular esperamos encontrarnos
con todo el arco parlamentario durante esa tramitación eskerrik asko castelo anderea

eta aurreko legealdian eta hemen aipatua izan den bezala al igual que en la legislatura anterior

en cuanto a abrir las puertas de la participación a la población y a la ciudadanía y se han

en aquella modificación de la iniciativa legislativa popular entre ellas ese número de firmas necesarias que bajaron de treinta mil a hamar mila pero hay que recordar que también eh bildu en aquel entonces solicitaba que dicha

fuera todavía incluso menos luego también se ha recordado aquí el tema del censo y el padrón

posibilitando a que las personas que vienen a vivir a esta parte de nuestro país también puedan participar de dichas iniciativas legislativas y luego otra cuestión que ha estado sometida hoy a debate aquí que son las cuestiones

traídas mediante iniciativas legislativas populares pero eh bildu sí que de alguna manera quiso poner una limitación aún más allá

haciendo unas aportaciones sobre los límites éticos de aquellas iniciativas legislativas populares para que no se diesen

del célebre maroto por lo tanto

de alguna manera consideramos que abriendo la posibilidad de debate y

nuevas aportaciones fue la de dar voz a los proponentes de dichas iniciativas y eso es algo que

hemos podido comprobar aquí con las dos iniciativas legislativas populares

escolar por lo tanto a esto atiende básicamente nuestro voto favorable a la oportunidad que se abre ahora para seguir mejorando y

que ahonden aún más en la democracia participativa en aquel entonces eh bildu trajo la propuesta de dar un último

exposición de dicha iniciativa y esa cuestión no fue acordada con el resto de grupos y nosotros consideramos que abriéndose esta oportunidad será uno de los temas que podamos traer aquí unas propuestas que

a exponer cuestiones o incluso en los plenos de control siempre tiene el último turno de palabra por qué no lo va a tener el pueblo

no van a poder tener ese último turno de palabra porque el tristemente asesinado parlamentario vasco santi brouard aquel veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro cuando fue candidato a alcalde al ayuntamiento de bilbao en mil novecientos setenta y nueve en aquellos comicios hizo célebre una frase que decía que

es el pueblo aquí se legisla para que luego el gobierno

ondorioak zer nolakoak izango ziren porque dijo es un juicio en defensa no de la legalidad

en defensa del marco político que hay

que quienes tienen derechos son los españoles que son los únicos que deciden y este es el marco que tenemos eta horrek argi

zer nolako justiziaren aurrean gaudela que está absolutamente politizada la justicia lo tenemos claro supeditada a intereses coyunturales del estado sobre todo como decía antes cuando aborda estructuras de poder azken hilabete hauetan justizia eta epaileak

hitz egiten egon garenean para mí es muy significativo que si los jueces hacen una huelga y se sitúan detrás de una pancarta en la que dicen que quieren ser

es muy significativo que sean ellos mismos quienes dicen eso porque con eso nos están diciendo que efectivamente no hay independencia y por qué no la hay porque a través de las diferentes reformas que se han ido haciendo en el consejo del poder judicial a la hora de elegir a los vocales lo que se ha pretendido es que efectivamente esa independencia no exista y que esas personas que allí se sientan sean

que están siempre en defensa del interés de

es decir que son más políticos que jueces profesionales y por eso los mismos jueces hablan de la falta de independencia

justiziaren deskonfiantza areagotzen da porque qué pasa y se preguntan las personas cuando los jueces no pueden sustraerse al impulso político de quienes los ponen

las sentencias que tenemos qué pasa cuando los jueces

en función de lo que creen y de lo que los que les ponen dicen que tienen que creer pues que tenemos las sentencias como tenemos y eso es algo que está también en boca de todas las personas eta gizarteak argi dauka gizarteak

el consejo general de la abogacía bere momentuan egin zuen ikerketa bat

sobre la justicia española es que es ineficaz que es ininteligible que es antisocial y que es

y que necesita una reforma integral pero dijeron más cosas el cincuenta por ciento de los encuestados dijeron que funcionaba mal

el sesenta por ciento dijeron que el estado de derecho en españa va por mal camino respecto a europa

que un pueblo democrático un país que quiere vivir en democracia necesita una justicia independiente y necesita una justicia que respete todos los derechos y todas las libertades

haga posible que esto sea una realidad y necesita que todo eso además tenga una estructura que permita llevar adelante

también queremos tener la capacidad para dotarnos de nuestras propias leyes para organizarlo y para poderlo poner en práctica el parlamento está hablando de un modelo nuevo de estatus y en este nuevo modelo de estatus hay y ha habido una discusión sobre esta cuestión y hay votos particulares y hay quienes plantean una cosa y hay quienes plantean otra nosotras tenemos muy claro que necesitamos un verdadero poder judicial que necesitamos un poder judicial de calidad

donde los derechos lingüísticos estén reconocidos y se puedan llevar a la práctica que sea verdaderamente eficaz que sea efectivo que tenga perspectiva de género que también en otras intervenciones hemos señalado que creemos que no tiene que

todas las actuaciones con justicia gratuita al servicio

más vulnerables una justicia no arbitraria en definitiva una justicia con una independencia real y que

derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas ante la ley horregatik aldarrikatzen dugu botere

y efectivamente es mucho mejor que mantengamos cada uno nuestras posiciones

no somos capaces de reivindicar un poder judicial propio para nuestro país cuál es la razón que nos impide decir

y por qué no estamos de acuerdo con esta circunstancia y evidentemente como no voy a hacer ese cambio ni modificación de esa parte de la propuesta es por la que ha sido así como otras veces ha sido más fácil imposible llegar a un acuerdo porque sé que en muchas de las cosas que yo he dicho coincidimos

estaríamos de acuerdo en la filosofía general no tengo ninguna duda pero no estamos de acuerdo en el punto fundamental por esa razón es por la que mantenemos nuestra propuesta

es la que ponemos a votación y lo que me gustaría ahora es escuchar

a la propuesta que nosotros hacemos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia

qué derrotero toma el debate porque al fin y al cabo es difícil creer que sea casual

a los políticos catalanes por lo que probablemente volvamos a hablar de cataluña en este parlamento ya sea de forma tangencial o central la novena vez en año y medio

todo apunta a que será gran parte del debate al margen de esto

ya que las deficiencias existentes del sistema judicial desde luego no son algo menor y es una cuestión que preocupa a la ciudadanía

vivimos tiempos políticos inestables a las puertas de una nueva convocatoria electoral

anunciada este viernes y tras haber sido tumbados en el congreso de los diputados los presupuestos más sociales que ahí se han podido ver no podemos obviar

que sufren ciertas instituciones está ahí es innegable que está ahí y dentro de ese contexto la justicia es uno de los poderes que peor

no hay más que ver la valoración de la ciudadanía sobre el poder judicial solo es necesario atender a estudios recientes para ver cuál es la percepción ciudadana sobre uno de los pilares fundamentales de una democracia el sociómetro publicado por el gobierno vasco en diciembre de dos mil dieciocho indica que el nivel de confianza de la ciudadanía vasca en la justicia es de un veintiocho por ciento

valoradas poco más que la confianza que tienen instituciones tan cuestionadas como puede ser

y por si fuera poco en su cota más baja de la serie histórica y con una tendencia descendiente que cae a plomo si bien nunca ha tenido una valoración alta

y es evidente que diferentes factores entre ellas muy especialmente las decisiones de carácter político han hecho que en los últimos diez años la justicia esté herida

a otro estudio el último de euskobarómetro los datos aún son peores

y la justicia queda entre las peor valoradas junto con la patronal

ha habido ataques directos a la libertad de expresión con actuaciones sobre artistas sobre tuiteros

como el jueves sentencias y actitudes machistas permanentes

interminable y hoy tampoco podemos obviar desde la discrepancia política con el procés la situación de agravio democrático de las personas presas por esta causa cuyo encarcelamiento nunca debió producirse

con acusaciones desproporcionadas y exageradas algo que no es solo nuestra opinión sino la de amnistía internacional

no soluciona nada y no puede ser el eje sobre el que afrontar el desafío catalán

aún más la solución del conflicto es un error continuar con esta estrategia de judicialización que solo puede conducir

de la justicia y a la degradación de la política un desprestigio que ya se vio con las resoluciones de bélgica y de alemania

si el supremo no enmienda su propia forma de proceder pero volviendo a la cuestión la crisis del poder judicial es grave oso

cómo vamos a pedir a la ciudadanía que respete la ley si una institución como el tribunal supremo no respeta la suya propia

sólido y confiable las consecuencias negativas serán siempre para los mismos la ciudadanía y la democracia y frente a los que se frotan las manos con el descrédito de las instituciones

y tratan de llevar esto a la imposibilidad por ejemplo de reforma del estado

reafirmamos en la búsqueda de soluciones reales y realizables

reformas constitucionales y políticas que hagan que nuestra democracia sea ejemplar elkarrekin podemos no nos relamemos por este problema al contrario nos preocupamos y de forma constructiva

con una justicia parcial patriarcal y sometida al poder político perdemos todos y todas es necesaria

la adopción de medidas de transparencia que permita conocer cuestiones

porque no nos equivoquemos no todos somos iguales ante la ley algunos juegan con ventaja y un ministerio fiscal sin recursos y al servicio del gobierno de turno

el consejo general del poder judicial debe contar con un sistema de elección directa que no condicione los nombramientos a los cambalaches políticos es necesaria una despolitización inmediata del tribunal constitucional

ni de las oligarquías económicas cómo no es necesaria una auditoría pública

del sistema judicial para garantizar su independencia y un servicio público y de calidad a la ciudadanía y desde luego es necesaria una justicia que tenga

es necesario terminar con procesos judiciales que culpabilizan a las mujeres víctimas de violencia es urgente terminar

que carecen de perspectiva de género y en definitiva acabar con una justicia que abandona sistemáticamente a las mujeres son muchos los cambios que necesita el sistema judicial y no son cualquier cosa estamos ante uno de los tres poderes fundamentales de un estado

que pueda hacerse con una minoría simple ni parece

que vemos cómo cambia de opinión cada día hoy más que nunca es necesario gobiernos sólidos políticamente con un proyecto de país claro con una mayoría plural

que le den estabilidad vista la votación ayer en madrid se demuestra que esto es urgente

de manera irresponsable se abre la puerta a un nuevo tiempo electoral

más oscuras de nuestra historia por eso hoy más que nunca es necesaria la construcción de mayorías progresistas en todos los niveles institucionales

hasta el gobierno del estado que permitan hacer políticas democráticas y de progreso y abordar reformas tan trascendentales como la del sistema judicial por último quisiera pedir la votación por puntos

ya que a pesar de no compartirla al cien por ciento creo que son varios los puntos coincidentes en los que elkarrekin podemos querría dar

señora goirizelaia ayer cuando tenía que presentar la intervención

y es verdad que detrás de esta proposición de ley hay una preocupación por lo que supuestamente motivó la retirada para luego volver a presentar la iniciativa

pues en fin que esto es lo que le pasa a eh bildu que aunque se vista de social abertzale se queda o sea yo creo que ese ha sido el resumen de su intervención le digo esto porque

porque el meollo de lo que aquí se trata y a usted no le ha costado nada llegar a él es el punto tres porque para usted es una euskadi independiente un poder judicial propio ya de por sí es garantía de independencia confunden una vez más y cuidado que ya se lo hemos repetido independencia del poder judicial con independentismo

o cuando hablan de la independencia del poder judicial que hablan de que sean los independentistas quienes determinen quiénes tienen que estar

judiciales y que las distintas resoluciones judiciales a ser posible les den la razón y esto no me lo invento yo porque usted ha invocado

en la exposición de su pnl a las bases que su partido y el partido nacionalista vasco han aprobado

he cogido la parte que hace referencia al poder judicial y la verdad es que no he encontrado una línea ni media ni entrelíneas y lo he mirado con cariño y con cuidado donde se puede interpretar

cosa de la que usted sabe perfectamente por eso no hemos intentado tan siquiera una transaccional mi partido discrepa de forma abierta y rotunda es que

ejercen ese poder judicial que son los jueces y las juezas lo que sí hay es un traslado casi mimético de lo que existe ahora bajo el mando de lo que ustedes llaman el sujeto político le diré más también me he leído el voto particular que eh bildu sabe usted mantiene sobre este tema y la verdad tampoco me ha aportado nada

tan siquiera está insinuado en ese sacrosanto acuerdo de bases así que ahí

hoy aquí porque más allá de la manifiesta inconstitucionalidad de la propuesta que usted nos trae no hay un solo dato sobre el que sostener que un poder judicial propio

y la segunda falsedad es que alguien que quiere hablar de independencia judicial posteriormente sentencie desde el poder político el legislativo en este caso

es bastante habitual por parte de eh bildu cuando se está disconforme con una resolución como podemos estar también otros lo que no podemos es en erigirnos en un poder sentenciador alternativo que es lo que hace la proponente sin afirmar sin ningún tipo de margen de duda para ella que el tribunal supremo

hizo una jugarreta y que obedece a la presión e intereses de la banca esto es una acusación en toda regla que usted como experimentada abogada sabe perfectamente dónde está el cauce para denunciar lo que yo creo que hay es un clara contradicción entre lo que decidió una sala y lo que resolvió un plenario algo difícil de entender y en eso nosotros nos hemos nos podíamos poner de acuerdo pero esa clara contradicción también la encontramos en la propia exposición que la señora goirizelaia

cómo explica que unos magistrados que como usted sabe son en sí mismos el poder judicial verdad hubieran dictado una resolución que sí compartía

lo que nos lleva a la tercera gran mentira de este debate y es que aquí no estamos hablando de independencia del poder judicial ni siquiera del interés de la ciudadanía de los consumidores

cuestionando la pluralidad cuestionando todo lo que tenga que ver con españa y desprestigiando un sistema

con todas las discrepancias que nosotros podamos mantener también con respecto a muchas decisiones de las que se hayan dictado una de las puntas de lanza para hacer posible que hoy por ejemplo aquí estemos usted y yo discutiendo de esto porque esos mismos tribunales avalaron el trabajo que usted señora goirizelaia hizo en su día para que el partido al que pertenece lo esté haciendo en contra incluso

o de esto no nos acordamos y la cuarta gran mentira es la paradoja de que hoy catorce de febrero algún portavoz me ha dicho qué curioso verdad es coincidencia hombre coincidencia coincidencia pues que estemos discutiendo una iniciativa que se registró a primero de mayo del dos mil dieciocho que la retiramos en noviembre para volverla a presentar de forma inmediata bajo un supuesto interés

yo creo que las urgencias de eh bildu no eran la de los consumidores

socialistas ya no habrá capacidad de interpretación de los gastos

por ningún tribunal al respecto eso se arregló desde el poder legislativo la urgencia

para sacarlas a conveniencia en este caso para hacerlo coincidir con el juicio del procés catalán

esto ya va de lo que conocemos que ustedes no aceptan ninguna decisión judicial que no les dé la razón y lo peor ni siquiera conceden la mínima presunción de inocencia a los magistrados salvo a aquellos que se hayan prodigado en algunos medios y tengan algunas tesis o mantengan algunas tesis que no les contradigan en exceso

como ustedes y eso es lo que más nos preocupa que sigan con esa mente estrecha que no

al grupo socialista no le gusta este juicio no le gusta que los dirigentes independentistas catalanes

en sus decisiones a situaciones que están fuera de la legalidad y que solo los jueces deberán valorar y no nos gusta que el anterior gobierno de españa se escondiera bajo las togas y renunciara a hacer política pero llegados a esta situación que es el momento en el que estamos lo que queremos es que los magistrados tomen sus decisiones valorando las pruebas que se presenten en el juicio oral que como usted sabe señora goirizelaia es como se hacen y como se deben

hagamos política por eso defendemos en nuestra enmienda algo sin trampa sin cartón sin doblez y sin terceras intenciones y además muy claro y usted lo sabía perfectamente

independiente que garantice el principio de separación de poderes entre el ejecutivo entre el legislativo y el judicial

último de garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía yo ya reconozco que esto resulta bastante menos emocionante que lo que usted plantea señora goirizelaia pero yo le digo que esto es mucho más garantista y eficaz en un estado de derecho

konklusioekin la formación política a la que represento

y lo reitero hoy que hay una larga y alarmante lista de casos en que las más altas instancias europeas

y los acusados a un juicio justo y por su falta de imparcialidad esta sucesión de varapalos judiciales debiera sonrojar a la administración de justicia del estado español es hora por tanto decíamos de que la administración de justicia española una profunda renovación de sus estructuras funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los derechos esto lo decía lo decíamos

al caso bateragune pero es perfectamente aplicable a lo que estamos viendo estos días lo reitero es hora de que la administración de justicia española

una profunda renovación de sus estructuras funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los derechos en el escrito de eh bildu

al bochornoso espectáculo en la sala tercera del tribunal supremo con el impuesto sobre los actos jurídicos documentados como se ha mencionado por la anterior portavoz

ha quedado periclitado superado por los acontecimientos ocurre lo mismo con alguno de los otros casos que se mencionan que usted menciona

y las actuaciones de algunas instancias judiciales y políticas han dejado en evidencia al sistema judicial y han puesto en entredicho su imparcialidad su dependencia de los partidos políticos su sumisión a los poderes económicos y financieros tal como dice elkarrekin podemos

y seguramente al peor momento de descrédito de la justicia en el reino de españa hala ere nik gaurko honetan

al fondo que también se convierte en una cuestión de forma o de metodología

como bien sabe hay en marcha una ponencia para la actualización del autogobierno de euskadi donde hay una mención al poder judicial y en concreto al consejo general judicial vasco con todos los matices que quiera

por tanto hay unas bases consensuadas y unos votos particulares presentados en concreto

su grupo ha presentado un voto particular concretamente a la base cuatro apartado

que habiendo culminado un trabajo parlamentario ciertamente delicado y habiendo designado un grupo de expertos para intentar acercar posturas y formular textos articulados se vaya

o suplantar sus quehaceres mediante acuerdos adoptados en esta cámara

teniendo en cuenta los votos particulares de otros grupos que están en las antípodas de sus posiciones y de las nuestras en esta materia no parece muy procedente ni prudente ni aconsejable forzar la máquina señora goirizelaia es más bien tiempo de engrasarla

dejemos a los expertos hacer su trabajo después vendrá la auténtica negociación en la que todos incluido el pnv y espero que eh bildu hemos de hacer un esfuerzo por incorporar al máximo todas las formaciones que se puedan a ese consenso

después del trabajo ese de cocina que hacíamos referencia y será el momento procesal para que su formación haga las consideraciones que estime oportunas

o cualquier otra cuestión pero será entonces y no ahora no pongamos el carro antes que los bueyes

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno buenos días a todos comenzaba el portavoz del partido nacionalista vasco diciendo el señor latxaga diciendo que no era fácil preparar la intervención de hoy y yo estoy completamente en contra de su opinión es muy sencillo lo único que necesitas es tener las ideas claras usted ha hecho un discurso en el filo de la navaja ni sí ni no ni todo lo contrario y yo de verdad le voy a exhortar desde ahora

porque yo sinceramente no tengo claro de qué nos está hablando a mí la proposición de ley que nos ha traído hoy a debate el grupo eh bildu

es una especie de ejercicio de lógica con dos premisas que termina en un tercer punto que es un desiderátum una conclusión

falsas que llegan a una conclusión que por lógica no podría ser más que también falsa yo no abogo por un poder judicial propio porque entiendo que ya lo tengo sería como pedir que quiero ser parlamentario vasco es que ya lo soy yo tengo un poder judicial

propio y me parece francamente vergonzoso el ataque que están haciendo ustedes a esos más de cinco mil quinientos jueces y magistrados que día a día trabajan en todos los juzgados unipersonales o en los juzgados colegiados resolviendo asuntos que llevan ante ellos los ciudadanos

aproximadamente usted ha subido aquí a decirnos que los propios jueces reconocen que no son independientes porque les ha visto detrás de una pancarta solicitando

o usted quiere torticeramente cambiar qué es lo que nos quieren decir todos esos jueces y magistrados que se respete su independencia no que ellos no son independientes que es lo que ha subido a decir aquí que ellos no son independientes yo

decir que ellos no son independientes piden respeto a su independencia hoy aquí no están respetando la independencia de jueces y magistrados con afirmaciones gruesas con afirmaciones falsas diciendo que esas personas

por cierto hay muchas sentencias que no nos gustan a los ciudadanos que no nos gustan a los operadores de la justicia y que no nos gustan a los políticos pero es que posiblemente tampoco gusten a quienes las firman por qué porque el deber de un juez no es dar la razón a quien él considere oportuno

esas leyes no son las más correctas no son las más justas o no están bien hechas y en eso igual debiéramos mirarnos el ombligo nosotros que somos un poder legislativo y que muchas veces no legislamos con claridad y con contundencia para que luego la aplicación de esas leyes para los ciudadanos se hacen sencilla

les dé la razón a ellos a una administración o entre los propios ciudadanos quizá la culpa es de cómo se legisla y no solamente de los jueces evidentemente de ese millón y medio

fiscales que hay en españa pues hacemos ya varios millónes de resoluciones que afectan a los derechos de los ciudadanos

ni yo las comparto evidentemente pero de ahí a decir que son todas machistas

de frenada o bien lo que quiere es construir un discurso de cara a la opinión pública diciendo que todos esos jueces y magistrados

ámbito de la sociedad en el que abunda el número de mujeres es precisamente el de la judicatura yo mientras oía las palabras del señor martínez estaba pensando en el palacio de justicia que tenemos aquí cerca

una mujer y un hombre yo no me atrevería a decir que sus resoluciones tienen sesgo machista como ha hecho usted señor martínez de verdad me parece una que usted mantenga públicamente ese discurso porque no es cierto

dice que son machistas que es diferente puede que haya preceptos del código penal que no le gusten

culpe a quien legisla no a quien aplica esa justicia insisto el poder judicial como todos los poderes es muy mejorable pero de ahí a hacer la crítica caótica en la que nos encontramos en este momento no puede venir aquí a cuento si no es precisamente por un interés espurio que es el de criticar los poderes del estado

se está juzgando a doce señores que llevaron a cabo determinados actos como autoridad públicas que eran como políticos que eran

a la ley y por eso se les juzga no se juzga a los políticos catalanes no se juzga a los cientos de miles de catalanes y no catalanes

en un tribunal que está respetando todas las garantías esperemos a que termine el proceso veamos qué dicen las sentencias y podremos criticar un procedimiento judicial no un millón y medio de procedimientos que se celebran aquí al año

de resoluciones del tribunal de derechos humanos castigando al reino de españa por vulneración de los derechos procesales

en el dos mil diecisiete seiscientos veintidós me parece que fueron recurridas al tribunal de derechos humanos

seis resoluciones de ese tribunal dijeron que efectivamente se habían vulnerado una innumerable lista señor latxaga seis de un millón y medio si usted se lee los ratios de

de las demandas que se someten a ese tribunal y de las resoluciones que tenemos resulta que estamos muy por debajo de la media

cero coma catorce asuntos llegan a ese tribunal del reino de españa la media

de los que llegan allí y de los que se dictan con resoluciones reconociendo la vulneración de los derechos humanos esa innumerable lista que dice usted

uno de los asuntos que se dictan señor latxaga eso no es una lista innumerable a mí también hay resoluciones judiciales que no me gustan pero no por eso voy a coger un caso particular voy a hacer una teoría general y voy a decir que el poder judicial es corrupto

se dejan llevar por los poderes económicos o por los intereses de los partidos políticos estamos diciendo que son corruptos porque no están cumpliendo sus obligaciones y están dictando resoluciones que no son justas sino que efectivamente están llevadas por intereses que son negativos que son espurios que van contra la ley

para eso tenemos un sistema penal garantista no lo siguiente de los más garantistas de europa y tenemos un sistema de doble instancia cuando un juez

normalmente siempre hay una segunda o una ulterior instancia

a la que llevar ese asunto para que sean otras personas diferentes quienes nos digan que efectivamente

son humanos y dictan cientos de miles de sentencias al año algunas lógicamente estarán mal hechas es normal y habrá jueces que sean malos malos jueces porque no tienen preparación o malos jueces porque tienen muy mala baba y dictan las sentencias que les da la gana llevados por otros intereses que no es el de la aplicación de la ley claro entre cinco mil quinientos pues alguno

mal o es que aquí entre setenta y cinco todos somos ilustres legisladores y todos somos fantásticos y nos dejamos llevar por unos principios propios del derecho natural para todo los comunes a todos los hombres o aquí cada uno viene a hacer su discurso como en el día de hoy que vienen a criticar la justicia simplemente porque el interés es pedir un poder judicial propio que es una aspiración política muy lógica y muy permitida dentro de un sistema de derecho como es el nuestro aquí puede venir alguien criticar a la justicia y decir que quiere

porque no podemos expresarnos ante los tribunales en euskera lo que es falso

que yo sepa aquí se pueden iniciar y tramitar los procedimientos

por ciento de esos procedimientos terminan aquí y se pueden celebrar en esa lengua pero

cuál es el índice de procedimientos que a voluntad de las partes se inician en euskera y se tramitan íntegramente en euskera porque igual resulta que no es un problema de poder o no poder
de querer o no querer que sea la voluntad de las partes la de llevar el procedimiento en un idioma o en otro y esa es otra cuestión bien diferente muchas gracias eskerrik asko

yo que pensaba que había venido súper bien disfrazada de lagarterana o de alguna cosa así y resulta que me ha pillado

me ha dejado alucinada la intervención hombre pues por supuesto que soy efectivamente pero soy exactamente igual que usted

y por esa razón exactamente igual y yo le respeto usted puede ser lo que le dé la gana y pensar como quiera pero por esa razón

y hablo del país que quiero tener quiero tener los tres poderes y quiero tener el poder judicial y usted me dice es que el pedir un poder judicial propio no es garantía de que la justicia vaya a ser

eso que no deja de ser como muy bien decía el señor ruiz de arbulo una reivindicación política legítima que gracias por reconocerme la posibilidad de poderla decir aquí

por lo menos hemos avanzado algo lo puedo decir que antes ni se podía pero eso evidentemente no quiere decir que simplemente con la reivindicación podamos hacer las cosas de otra manera habrá que ver de qué normas y de qué cosas nos dotamos para hacerlo pero lo que sí está claro es que con lo que tenemos ahora

es todas las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa cuestiones que usted también reconoce que pasan porque usted también es consciente de que pasan todas las cosas que aquí han salido y aquí casualidades en este mundo pues hay algunas pocas o muchas cada uno presenta las

pero evidentemente lo que yo le pediría cuando hace usted interpretaciones de las cosas es que se lea bien todo y hay un

sacamos solo la parte que nos interesa del todo

cuando intervinieron algunas de las acusaciones diciendo un trocito de la sentencia olvidándose del contexto esto es exactamente igual

y se dará cuenta de que estamos haciendo lo que estamos haciendo en todos los sitios gauza bat

batzen dugu eta horregatik gero hori abiapuntu horrekin planteatzen dugu planteatzen duguna y me extraña mucho que la negativa a poder pactar o poder acordar la cuestión que nos ocupa como el fondo sea una cuestión metodológica la verdad es que

pero que por una cuestión metodológica que no va esta propuesta en su texto ni en su contexto en contra de ninguna metodología

en el otro debate absolutamente nada no va en contra de nada porque es una reivindicación

algo que queremos tener pues ya me dirá usted eso cómo va en contra de la metodología

hacer una reivindicación en unos términos pero es que esa reivindicación

el señor lehendakari si se la oí yo sentada en el tribunal superior de justicia del país vasco se lo oí allí delante de todos los magistrados

los poderes que ahí estaban reivindicó un poder judicial propio

al inicio del año judicial en el país vasco le oí al señor lehendakari decir esto con lo cual entiendo que estará de acuerdo usted con el lehendakari supongo igual no no lo sé

exactamente lo mismo y señor ruiz de arbulo la verdad es que mire usted sí que es claro y dice las cosas con claridad usted ha dicho yo no quiero un poder propio ya tengo el

pues ya está a partir de ahí podremos discutir sobre lo que pensamos de la justicia sobre la sentencia sobre esto y sobre lo otro

lo que piensa y me ha dicho que eso es así ahora sí que quiero hacerle una puntualización no hacemos una relación directa en que el poder judicial propio garantice que los juicios se puedan hacer en euskera y lo que usted nos dice en relación con que ya se pueden hacer eso no es verdad

sabe porque es profesional de la abogacía que la cuestión más importante en todos los procedimientos judicial es la oralidad

de oralidad y el principio de inmediación principios que se rompen absolutamente con una traducción cuando alguien no entiende lo que alguien le está diciendo

se rompen los principios le pondría mil ejemplos de que a ustedes aquí hay veces que votan mal

porque no entendieron lo que les decía el traductor traslade usted eso a un juicio traslade usted eso a un juicio y verá la diferencia

por una vez comparto bastante de su intervención pero sí que es verdad que me parece ahí una cosa que es curiosa

que critique usted que el poder político cuestione sentencias judiciales cuando el propio gobierno de pedro sánchez fue el que cuestionó la sentencia de la manada o de las hipotecas

que el tema se ha centrado bastante se ha centrado en una cuestión concreta que es

en el que discrepamos y por el cual hemos pedido una votación por puntos

en explicar también el porqué de nuestra discrepancia partiendo del hecho de que

que se trata de dónde se ponen las prioridades

yo creo que por primera vez o por una vez más

de acuerdo en buena parte del diagnóstico de los problemas de la justicia por lo menos

evidentemente y efectivamente hay un problema de separación de poderes hay un problema de imparcialidad hay un problema de independencia

pero obviamente no coincidimos en todas las soluciones

antes decía que algunos siempre quieren llevar el agua a su molino cosa que es legítima pero nosotros en este caso sí que no vamos a seguir ese camino por eso

que ya discutimos además en la ponencia de autogobierno como decía el señor latxaga y que las posiciones están clarísimas en los documentos

que sobran en una iniciativa como esta como ya bien ha dicho la señora goirizelaia

no era el de mejorar la justicia o de alcanzar un acuerdo en este sentido sino

y dejar todo lo demás en una parte secundaria dejar en una parte secundaria la calidad de la justicia dejar en una parte secundaria

de la democracia y la separación de poderes porque al fin y al cabo tener más competencias o un poder judicial propio por sí mismo no garantiza

de hecho tenemos competencias en el ámbito de la justicia con las que se podría hacer más de hecho se podría hacer mucho más

solo los gobiernos de carácter progresista pueden garantizar verdaderos avances hacia la igualdad y erradicación de violencias machistas y solo los gobiernos de carácter progresista han defendido y van a defender las necesidades

por las mujeres hasta hoy y las mejoras necesarias para un sistema judicial eskerrik asko eskerrik asko

lagarterana yo lo que le he querido decir es que usted no me cabía ninguna duda que lo primero que es

sabemos tan bien perfectamente a qué nos dedicamos y eso de coger el trozo para utilizarlo en nuestro favor lo hacemos perfectamente las dos tampoco le voy a dar aquí

lo primero soy socialista eso es cierto soy europea soy española pero también soy vasca le pese a quien le pese le guste a quien le guste además soy una vasca más libre desde hace no demasiados

lo único que le he querido decir cuando usted presenta algunas cosas y las trae en el momento que le parece interesante u oportuno es que lo que eso significa es que usted es una oportunista

en intereses que nada tienen que ver con ese barniz social que usted intentó meter en el párrafo dos de la iniciativa es más otro tipo de intereses que ha quedado muy bien porque así nos ha contado usted que ayer estuvo donde estuvo pues perfecto los demás no hemos necesitar ir

perfectamente yo creo que hemos sido claros

más de un grupo sabemos lo que no compartimos fíjese si somos claros que no ha hecho falta ni ponernos en contacto de forma previa porque como usted bien dice para perder el tiempo no estamos y donde no

acuerdo de bases en ese aspecto que ustedes han centrado yo lo único que he dicho

no compartir la resolución que dicta un tribunal es muy legítimo se puede no compartir

es posteriormente dictar sentencia desde la tribuna de un político eso es lo que no

nos corresponde nos corresponden otras capacidades y es probable que igual la modificación de los sistemas de elección de los órganos de gobierno del poder judicial es algo que sí está en manos del poder legislativo igual no de este igual no de este porque aquí venimos a hablar muchas veces de cosas que igual allí

nos equivocamos de foro o de pista a la que tenemos

de discurso bruto con respecto a la falta de imparcialidad y de independencia del poder judicial afecta

y ustedes no excepcionan a ninguno todos son imparciales todos son dependientes debajo de no sé muy bien qué por tanto yo creo que no debemos desde las tribunas políticas incrementar ni acrecentar

instituciones porque eso es que nosotros mismos aceleremos una devaluación en vez de ponerle freno coto y posibilidad de modificación porque está dentro de nuestras capacidades es verdad que nosotros no pegamos botes en ningún asiento ni respingamos señor ruiz de arbulo

cierto cuando se dice que no es posible hacer juicios en euskera sabe la señora gorizelaia que falta a la verdad porque se intentó además

abogados que hablaban en euskera y donde tuvimos la gran pega es que el cliente el administrado no quería que el juicio se desarrollara en euskera y contra eso tampoco se puede ir eso es algo que también lo conoce la señora goirizelaia pero lógicamente pues de eso

a partir de ahí en ese momento se acaban absolutamente todos los problemas y tendremos imparcialidad tendremos eficacia tendremos rapidez tendremos justicia lo tendremos todo lo que les dije

eta nik uste dot cuando el señor cosidó

que había participado en las negociaciones para renovar el poder judicial

no habla muy bien de la división de poderes en españa ni habla muy bien

política a la hora de elegir miembros del consejo general del poder judicial se está autoinculpando de alguna manera con ese whatsapp en ese

designar los vocales eso sí que le lleva a la justicia española

a un desprestigio a su vez el magistrado marchena

del consejo nombrado sin todavía haber sido

y en su comunicado creo que puso de manifiesto de alguna manera que pues alguna de las razones tenía que ver con presidir la sala segunda

tampoco prestigia para nada esa división de poderes que usted predica usted ha dicho aquí que los estándares europeos de alguna manera

en cuanto a los derechos humanos en cuanto a los derechos procesales de los ajusticiados y demás pues esos

de alguna forma ponen de manifiesto esa independencia judicial de la que usted hace gala pero tampoco hace muy bien

hace un par de días en una cuenta oficial en la que se dice si con los ajusticiados en ese proceso que está teniendo lugar ahora mismo el tribunal supremo

se dice si están ahí sentados es porque había un gobierno del pp eso no hace muy bien no habla muy bien de la división de poderes cualquiera que tenga ojos y quiera verlo lo ve ahora me voy a

usted en su primera intervención no sé si le ha

lo que quería es retratar a los grupos de esta cámara entonces

es básicamente lo que quiere no quiere otra cosa más que eso busca la foto ni la división de poderes ni los derechos humanos ni los derechos fundamentales busca básicamente eso

usted sabe que los planteamientos que se han llevado a la ponencia de autogobierno por parte del partido nacionalista vasco no son planteamientos de máximos desde el punto de vista de autogobierno que tiene el partido nacionalista vasco usted lo sabe y consciente de ello perfectamente y

lo que queremos con las bases que se han aprobado y con

es que de alguna forma enganchar con la propia constitución española porque pensamos que hay una singularidad de los territorios

amparado por el propio tribunal constitucional en ese sentido apelo otra vez a dejar un poco los maximalismos que tengamos cada cual

un esfuerzo por alcanzar un marco que pueda caber dentro de la constitución

que usted se sorprenda porque yo

porque usted pueda subir a esta tribuna y decirnos que quiere un poder judicial propio que quiere un estado independiente mire yo llevo

en política unos cuantos pero siempre he defendido eso y mis compañeros que llevan más tiempo en política siempre hemos

de todos los ciudadanos que usted pueda decir lo que piensa de la misma manera que eso lo defendían muchos jueces fiscales y magistrados que dejaron su vida en ello y en aquel momento usted no estaba en el mismo bando no no lo estaba cuando nosotros defendíamos la libertad el poder expresarse usted no defendía lo mismo

que es muy diferente es muy diferente

muy distintos señor latxaga usted me habla de tuit usted me habla

yo le hablo de las estadísticas del consejo general del poder judicial por cierto no confunda consejo general del poder judicial con poder judicial que son cosas distintas y así lo ha hecho en la tribuna no sé si por error o por la velocidad de este tiempo que nos constriñe

cada uno tiene su opinión y en este sistema y en este país podemos defenderlo libremente fíjese si podemos defender libremente nuestras posiciones que el otro día el propio lehendakari dijo que después de oír las cuestiones previas que había en el juicio que se iniciaba en esta vista

en el tribunal supremo donde se está juzgando a una serie

parlamento de cataluña por la posible comisión de un serie de delitos

los discursos de las cuestiones previas que habían planteado los letrados de la defensa dijo que el juicio tendría que terminar allí eso es una posición política que todos

tenemos derecho a hacerlas pero jurídicamente es una barbaridad insigne porque es una patada a nuestra décimonónica ley de enjuiciamiento criminal porque después de oír a las partes de la defensa que han planteado unas cuestiones previas habrá que oír a la acusación que tiene algo que decir no podemos terminar ese juicio

correcto para que sea completo y para que el tribunal de derechos humanos no tenga que hacer una salvedad sobre los derechos de las partes del procedimiento tiene que tener una práctica de una prueba y finalizará en una sentencia puede ser un desiderátum decir eso pero eso puede ser de alguna manera tratar de incidir en la libertad de los siete jueces siete magistrados

cómo termina el procedimiento señor martínez usted representa desde mi punto de vista un partido antisistema y lógicamente tiene que venir subir a la tribuna y sin ningún tipo de argumentos sin ningún tipo de dato realizar una crítica

magistrados jueces o magistrados de sala de audiencia o de

ya veo que usted no ha cambiado para mí insisto representa a un partido antisistema para otros puede ser muy útil para determinadas negociaciones para mí lo siento no porque no compartimos

en el primer turno no me ha dado tiempo a explicar cuál es la posición de mi grupo respecto de la última de las enmiendas que es la que han presentado los grupos del gobierno y

en ese primer turno que se me explique exactamente qué es lo que dice porque todos defendemos un sistema de separación de poderes

los derechos de los ciudadanos pero lo que ninguno de los dos grupos ha querido mojarse y ha querido decirnos de los dos grupos que han

cuál es ese sistema es el que tenemos es ese el sistema que tenemos ustedes defienden el sistema que tenemos señor latxaga

y como no me lo ha contestado y su discurso me parece que va por otro sitio la intervención del lehendakari del otro día va por otro sitio determinadas actuaciones de su grupo de su partido

en el voto de esa proposición porque me parece que usted no ha querido mojarse no nos ha dicho qué es realmente lo que piensa si ese sistema independiente con separación de poderes y que garantice

otro que quiere crear usted no se sabe cuándo dónde en qué condiciones y de qué manera por eso

mi grupo votará en contra gracias eskerrik asko